foru arau bat en dos mil siete en el territorio histórico de bizkaia sus juntas generales por unanimidad la ley siete barra dos mil siete sobre la recuperación de ayudas del sector público foral en el supuesto de deslocalización empresarial es una ley que está en vigor es una ley que no ha tenido ningún problema jurídico que no ha tenido ningún recurso sobre cuya

jurídico general nadie ha puesto ninguna duda y que se ha aplicado además y con éxito

en nuestro territorio existe una fuerte exposición del tejido industrial al capital foráneo hay más de

extranjeras asentadas en el país cosa que es normal y positiva y no es

en otros territorios no es una excesiva dependencia pero aun así es una parte muy importante

la que se asienta o la que está en manos de empresas de carácter multinacional supone más del diez por ciento del empleo privado y aporta al producto interior bruto aproximadamente

no son las empresas multinacionales las únicas susceptibles de afrontar o de emprender procesos de deslocalización también ha habido incluso casos aquí de empresas autóctonas que han tomado ese camino de la deslocalización pero sí es cierto que estas empresas tienen un nexo más frágil con el territorio y tiene una serie de facilidades por la estructura de sus empresas por sus recursos financieros y jurídicos por el hecho de que

están ya asentadas en un conjunto de territorios son estas empresas las que tienen más fácil el recurso a la deslocalización y porque además muchas veces más allá de proyectos con el arraigo de proyectos que vayan más allá del puro beneficio mercantil son empresas que se guían única y exclusivamente por el despiadado análisis del balance de resultados y la búsqueda de rentabilidad a corto plazo les hace que no le suponga ningún problema

a lugares donde esa rentabilidad pueda ser mayor gaur proposatzen

es una especie de contrato de permanencia cuando alguien hace un contrato con una compañía telefónica es habitual ahora ya menos pero antes era muy común que se le regalara por ejemplo

no está para hacer regalos sino para ganar dinero se le pedía un compromiso de permanencia durante un determinado número de años

ofertar a las empresas un entorno favorable para que se asienten ayudar a ese asentamiento ayudar a las necesidades cotidianas que puedan tener las empresas

pero siempre condicionadas esas ayudas a un plazo de permanencia de diez años de tal forma que si en ese periodo o en un periodo posterior a diez años a la recepción de una ayuda

tuviera la tentación de deslocalizarse se tuvieran que devolver todas las ayudas percibidas era también una declaración de intenciones sobre el carácter vigilante de la administración sobre

ayudas que no se dan gratis et amore que no se dan de forma incondicional sino que se deberían dar

expresa y regulada por ley de permanencia en el territorio

control también somos favorables a que se apoye el desarrollo empresarial pero no queremos regalar dinero a las multinacionales si luego se van a marchar con el dinero calentito y sin haber establecido una permanencia en este territorio

de forma estable porque la amenaza de la deslocalización no es como en aquella película de star wars una amenaza fantasma

es una amenaza que se está produciendo aquí en el territorio vasco en el conjunto de europa y de alguna manera en el conjunto de los países que podíamos llamar más desarrollados en términos económicos porque es una tentación para muchas empresas deslocalizar a países con unos menores costes productivos con unos menores costes laborales con unos menores controles medioambientales etcétera etcétera y por eso para hacer frente a esa tentación es importante buscar mecanismos para fomentar el arraigo de las empresas

directa en el capital el fundamental yo entiendo que tienen que ser la oferta de un ecosistema completo

de algo que hemos repetido en muchas ocasiones tenemos que atraer a las empresas ofreciéndoles ese ecosistema

trabajadores bien preparados bien formados ofreciéndoles ayudas y ofreciéndoles un entorno adecuado ofreciéndoles

amable y un entorno en el que esas empresas puedan desarrollar su actividad productiva y de una forma adecuada a través de ahí es donde hay que atraer a las empresas y si en un momento dado también hay que poner alguna ayuda

esa ayuda puede prestarse pero siempre con control y siempre garantizando que esa empresa va a seguir ligada al territorio como decía esa tentación de deslocalización se ha producido en muchos países y no somos los primeros en hacer frente o en tratar de

solo en el estado español en los últimos meses ha habido dos casos que han ocupado yo creo que bastante espacio en los medios de comunicación y que a estas alturas serán más o menos conocidos por todo el mundo uno el de la multinacional eólica vestas y otro el de la empresa productora de aluminio alcoa vestas anunció la intención de abandonar el territorio del estado español donde está asentado después de haber recibido hasta once millónes de euros en ayudas

la situación es algo más compleja pero fuentes oficiales del propio gobierno español hablaron de que las bonificaciones al precio de la energía eléctrica que había percibido esta empresa alcoa en los últimos diez años ascendían a mil millónes de euros

hacen uso muy intensivo de electricidad hacen uso que esta bonificado y hasta mil millónes se le había rebajado el precio de la factura de la luz

deslocalizarse y trasladar su producción a países con menores costes aquí en euskal herria también hemos tenido casos sangrantes como por ejemplo el de la empresa incoesa en bizkaia o el de la empresa siban también

anunció su intención de trasladarse desde bizkaia

beneficiarse de una serie de ayudas que en ese momento estaba ofertando el gobierno cántabro para el asentamiento de nuevas empresas estamos hablando del año dos mil quince en ese momento ya estaba en bizkaia en vigor la ley contra las deslocalizaciones

está presentando en esta cámara y la diputación foral de bizkaia su diputado

anunció la apertura de un expediente para obligar a esta empresa para que en el caso de que se materializara la deslocalización tuviera que devolver

de la diputación foral en años precedentes y esta simple medida esta apertura de expediente

evitó que siban se marchara de bizkaia en este parlamento hemos

que nos ha hecho volver nuestra mirada más de una vez sobre esta cuestión un caso reciente del año dos mil diecisiete es el caso de la empresa vizcaína o asentada

esta empresa decidió deslocalizar su producción y marcharse a la india para ello realizó una serie de operaciones de ingeniería financiera para debilitar la planta de ortuella y bueno no es cuestión de hablar en detalle de este tema pero

el parlamento rechaza la deslocalización de actividades productivas basada en simple conveniencia empresarial de obtención de un mayor beneficio económico y a continuación el parlamento decía el parlamento vasco insta al gobierno vasco a contemplar en los protocolos de relación a seguir con las empresas

medidas contra las deslocalizaciones como dirección y prioridad dentro de la normativa de la unión europea este último punto recogía una resolución también aprobada en el marco del debate del plan de industrialización un mes antes que iba en el mismo sentido y era

legea laburra da eta zehatza podíamos decir que hay más contexto que texto en esta ley porque como decíamos anteriormente

muy preciso y muy concreto la devolución de las ayudas de las empresas que se deslocalicen horregatik legea antolatuta dago soilik bi kapituluetan guztira zortzi artikulu eta

las limitaciones y medidas antideslocalización recogidas en los reglamentos europeos

cualquier condición adicional que superase el marco reglamentario europeo en materia de ayudas a la inversión y o al empleo pondría nuestra región y a nuestras empresas en inferioridad en condiciones competitivas respecto al entorno hau da behingoagatik

eredu produktibo eskubidetan oinarritzen dela bultzatzea está diciendo el gobierno vasco que la diputación de bizkaia que tiene en vigor una normal similar a esta

está diciendo el gobierno vasco que con el voto favorable del pnv y del partido socialista

ha deteriorado su competitividad exigiendo y poniendo en vigor una ley similar a la que hoy ponemos encima de la mesa cuando el diputado de promoción económica de bizkaia abre expediente a siban por la deslocalización

de ayudas previamente concedidas en el caso de que se deslocalice está perjudicando

el pnv y el partido socialista han estado durante diez años permitiendo

que no son los mismos argumentos que escuchamos a la derecha más liberal cuando se trata de subir por ejemplo el salario mínimo que vamos a ser menos competitivos fijaros

con la subida del salario mínimo y desde luego se vio que estaban dando argumentos falsos

ni la subida del salario mínimo destruyó la economía ni generó más paro ni generó

se le aligeraría un poco el bolsillo en beneficio de la mayoría aquí nos vuelven a decir que es dañar la competitividad exigir a las empresas responsabilidad

dañar la competitividad en qué espejo queremos mirarnos cuando hacemos este tipo de dictámenes yo tengo una duda no sé si el gobierno vasco y no sé lo que es más preocupante además si ha hecho este dictamen como venganza por una serie de derrotas que ha tenido aquí en el parlamento y decir bueno si yo no saco mis presupuestos y mis leyes voy a vetar la capacidad de eh bildu de sacar adelante leyes o

una venganza un tanto infantil o si es que realmente están en estos postulados no liberales sino ultraliberales porque las derechas en otros países de europa se preocupan por la defensa de sus empresas y de sus industrias las derechas en países

gente como trump o salvini que no creo que sean ejemplos de nada pero

el señor macron si tiene que nacionalizar un astillero va y lo nacionaliza será muy liberal

y predica liberalismo a diestro y siniestro pero cuando hay que nacionalizar un astillero lo nacionaliza

anuncia que está valorando fusionarse con fiat y esto es una noticia de esta semana el estado francés que es propietario del quince por ciento de renault y que no está ahí de convidado de piedra

que no está ahí para no hacer nada está ahí para velar por los intereses de la ciudadanía del estado francés

y voy a cerciorarme de que esta operación dentro de toda la libertad de empresa que se quiera pero que esta operación no dañe los intereses ni del estado francés ni de los ciudadanos

de derechas pero es que aquí hay algunas derechas que son más liberales que los partidos liberales son más papistas que el papa

yo es que no es que esté a la derecha de la socialdemocracia en el estado español es que

que las empresas sean obligatoriamente en un porcentaje propiedad de los trabajadores los laboristas han dicho que van a nacionalizar el sector energético parcialmente incluso y por la parte que pueda tocar a este país por la referencia que una parte de iberdrola el que opera

nacionalización de empresas energéticas propiedad compartida por los trabajadores y ustedes aquí se echan atrás porque

un dictamen de un gobierno que dice que eso daña la competitividad como decía antes no sé si es una pataleta o si realmente

están castigando al ciudadano y están castigando los derechos de los trabajadores y trabajadoras a tener mejores instrumentos para defender sus puestos de trabajo no sé exactamente por qué

resulta que evidentemente en esta defensa del liberalismo

se han encontrado en el camino con el partido popular para cerrar esa pinza conservadora que una y otra vez en esta cámara se opone al avance

muchas gracias señora presidenta señor casanova no sé en qué tipos de derechas de todas esas que ha citado usted nos encuadra o me encuadra a mí en cualquier caso

nos propone y usted nos ha dicho que esta proposición de ley que nos trae viene a llenar un vacío y yo le digo que lo que viene

a empeorar algo que ya existe es decir porque esto que usted plantea ya lo tenemos regulado lo tenemos regulado hace más de veinte años

que el gobierno vasco admitiera que cualquier subvención o ayuda tuviera que estar regulada por ley para que todos los que

tengan los mismos derechos de participación en igualdad de condiciones para acceder a las ayudas del gobierno vasco pero ya se hizo usted nos dice en el artículo uno

se pretende garantizar que las subvenciones que reciben las empresas sean para realizar una aportación económica todo esto

en el título sexto artículos cuarenta y ocho y siguientes del decreto legislativo uno barra noventa y siete de principios ordenadores de la hacienda del país vasco esto ya lo tenemos cuál es la novedad que usted nos plantea

es que cuando una empresa incumple lo que usted propone por ejemplo la deslocalización que devuelva el dinero

bueno pues yo le voy a decir cómo lo tenemos regulado algunos que no sé si somos tipo trump o qué somos verdad pero lo que tenemos planteado en la ley

se le puede poner una multa por incumplimiento de las obligaciones que va

en las muy graves multa del doble al triple de la cantidad indebidamente obtenida es decir

más el doble o el triple de esa cantidad si es grave

además de prohibición de contratar con la administración pública del país vasco durante tres años seis años

es decir las sanciones que tenemos previstas en la ley de subvenciones de esta comunidad autónoma hace ya muchos años son muy superiores a la que usted nos plantea en su proposición de ley y yo

motivo que hay es que usted diga que todas las ayudas a todas las empresas

y tenemos que poner los requisitos en la ley pero yo añadiré que tampoco puede estar de acuerdo porque todas las ayudas no son iguales ni para las mismas cosas

que evidentemente no pueden tener los mismos requisitos todas las ayudas contempladas en una ley

y como usted dice hace ya muchos años este parlamento le dijo al gobierno que pusiera esas cláusulas y yo le voy a citar solo dos de las últimas

dos mil dieciocho programa de subvenciones para el impulso en las zonas de margen izquierda

artículo dieciséis punto doce obligaciones

asumir el compromiso de no incurrir en deslocalización empresarial entendiendo como tal el traslado fuera de la comunidad autónoma del país vasco de todo o parte de la producción de la beneficiaria de todo o parte de cualquiera de las partes usted no plantea de todo o parte usted plantea

porque dice el traslado de todo o algo significativo

o una reducción significativa en la normativa que nosotros tenemos es todo o parte y eso ya es causa de incumplimiento y le puedo citar otra que sería la del departamento de desarrollo económico la orden de veintisiete de junio de dos mil dieciocho del programa gauzatu industria que tiene exactamente la misma cláusula

y luego viene como obligación no incurrir en deslocalización empresarial etcétera

ya lo tenemos por eso nosotros vamos a votar en contra porque no entendemos que se esté planteando vamos sí lo entiendo entiendo lo que usted plantea pero yo le digo que lo tenemos ya regulado y mejor regulado lo que yo ya no entiendo nada es la respuesta del gobierno vasco

señor erkoreka ya que usted nos la ha remitido sí me gustaría que el gobierno vasco no explicara

sí claro que son adecuados y las tenemos por qué dicen que cualquier condición adicional qué pasa que la cláusula antideslocalización

adicional pues si la tenemos si la tenemos si la ponen ustedes o sea a qué viene esto y luego punto dos en todo caso será dicha ley

ya está regulado cómo que habrá que regularlo por ley entonces yo aquí me tengo que hacer una pregunta

la propia normativa que tiene en la materia o el gobierno está previendo traernos un proyecto de ley

por ejemplo es lo único que me cabe interpretar de esta respuesta del gobierno vasco y sí me gustaría que el gobierno vasco nos respondiera porque evidentemente es importante

nos coloca el señor casanova pero estaremos en contra si esto es lo que pretende el gobierno

si nos va a traer esto que se intuye de esta respuesta

y además la pactamos entre todos hace ya muchos años y en cualquier caso señor casanova para evitar las deslocalizaciones el tema no son tanto las leyes

no para que no se vayan las que tenemos para que vengan empresas hay que hacerlo atractivo con una fiscalidad adecuada a lo que ustedes se niegan

tiene que tener unos servicios adecuados comunicaciones adecuadas a lo que ustedes se niegan bueno no le voy a recordar que se oponen a cualquier infraestructura que se plantea hacer en este país

y evidentemente tiene que haber una estabilidad institucional y el nacionalismo no es precisamente una máquina de atraer empresas de fuera a un territorio donde lo que se está planteando

y así llevamos más de diez años en los que parece que no atraemos a nadie

sociedades hemos mejorado algo tenemos una conflictividad usted decía

en fin tenemos una conflictividad laboral que no sé si es favorable o amable pero vamos

y desde álava solo por el entorno más amable y favorable sindical y usted también lo conoce

de verdad le preocupa la deslocalización y atraer empresas pues tendrían que cambiar ustedes bastante bastante

que nos hacen o nos traen a este parlamento porque todo lo demás y el discurso que usted nos ha hecho pues es mucho parlez vous nosotros no queremos que se deslocalicen pero oiga todas sus propuestas van para que se vayan nosotros nuestras propuestas son contrarias es para que se queden y para que vengan otras

fiscalidad servicios y evidentemente estabilidad institucional eskerrik asko damborenea jauna

bueno no pensaba salir pero muy brevemente por varias alusiones que se han hecho

o sea que lo que hay es más exigente que lo que pedimos y lo que pedimos según el gobierno daña a la competitividad por tanto lo que hay es el apocalipsis para la competitividad eso es un poco el razonamiento que usted ha hecho usted no se ha contradicho no porque usted ha dicho ya hay más es el gobierno el que ha dicho que lo nuevo dañaría la competitividad y usted añade no no es que lo que hay está por encima de lo nuevo entonces

por razones yo creo que distintas pero bueno han sumado los números

es que hay otro tipo de cláusulas y otro tipo de propuestas que todavía van más allá esta ley no limita por arriba esta ley lo que hace es poner un suelo es decir una serie de exigencias mínimas y en algunos aspectos como por ejemplo el que usted mencionaba cuando se hablaba de traslado significativo premeditadamente lo que hacemos es recoger en su literalidad

porque a veces en nuestra ingenuidad pensábamos que si una ley

a esos partidos les resultaría prácticamente imposible negarse a la tramitación de una ley que viene a decir lo mismo que han votado ello que viene a decir lo mismo no que dice lo mismo que han votado ellos

me he referido a ello que quizá haya otra serie de condicionantes distintos a los que hacen referencia a la propia ley en

que hayan llevado al gobierno a buscar una serie de escusas para negarse

nosotros lo que proponíamos es que de forma sistemática se estableciera un protocolo que como mínimo estableciera lo que establece esta ley y que a partir de ahí otra serie de cláusulas y otra serie de medidas podrían elevar ese tope pero al menos

una oportunidad si realmente están en la línea que han venido aquí a defender

hubieran podido introducir una serie de propuestas nosotros también nos contuvimos

en el sentido de no ir tan lejos como quisiéramos haber ido en aras precisamente a que hubiera un consenso mínimo por lo menos para que la ley pudiera

en el tope de nuestras demandas pero sí con unos contenidos mínimos aceptables

se podía mejorar y se podía elevar en cuanto a exigencia a lo largo del debate

no solo tienen un problema con respecto a que a las empresas que realmente materializan la deslocalización las deslocalizaciones suponen una espada de damocles que muchas veces se utiliza en la negociación colectiva para frenar las demandas de los trabajadores precisamente con esa amenaza que siempre pende ahí es decir bueno como no me guste lo que me estáis ofreciendo me cojo y me largo es un poco como cuando eras pequeño

pitarle penalti al dueño del balón porque podía coger picarse cogerse el balón y se piraba

que tuvieron que aceptar pulpo como animal de compañía porque si no el dueño del juego también se marchaba y eso es lo que muchas veces hacen las empresas lo tomas o lo dejas

en muchos ámbitos industriales de este país es que el empresario diga bueno un montón de sitios que estarían encantados de acoger a mi empresa y ya de esas partimos aparte de otra serie de medidas que se han introducido para desequilibrar todavía más a favor

debates anteriores concretamente entre otros el de general electric

no lo voy a repetir solo es que claro yo también quiero un entorno amable y una fiscalidad adecuada pero creo que tenemos diferentes conceptos

yo creo que una fiscalidad adecuada es aquella que equilibra la imposición fiscal con la posibilidad

económica que tenga un beneficio real porque el beneficio también

y la amabilidad como decía no es que los trabajadores traguen lo que sea

cualificadas que haya un sistema de investigación que haya un sistema de educación que haya un sistema de proveedores

alrededor de la empresa que se asienta que precisamente le pueda otorgar todo aquello que necesita

en el anterior debate siempre va a haber alguien que pida menos impuestos

y en esa competencia ahí sí que vamos a perder siempre y por tanto habrá que esforzarse ser buenos en aquellos que podemos ofrecer compatibilizando ese entorno amable para el desarrollo

y a tener un sistema de servicios públicos financiada con una fiscalidad adecuada eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

muchas gracias señora presidenta hombre yo tampoco pensaba salir pero al final dice esta ley

a la que está vigente a ver todas las leyes se pueden mejorar pero en su propuesta yo no veo ninguna mejora de hecho si hubiera tenido alguna mejora hubiera enmendado los artículos vigentes para decir esto queremos modificarlo así para que mejore

que hace su propuesta política para decir me preocupa mucho la deslocalización de las empresas lo cual es mentira porque ninguna de sus propuestas en sus planteamientos es para que se quede ninguna o para que venga ninguna de fuera claro claro y me dice

la fiscalidad vaya vamos a ver dublín irlanda

española muy independentista por cierto el dueño y se largó a dublín por qué

por qué se traslada a dublín estando en pleno procés para la independencia alguien tan independentista

a lo mejor porque sus colegas allí le abrasan a impuestos porque se va de barcelona a dublín a usted no le da nada que pensar que más de dos mil empresas se fueran de cataluña

no le da nada que pensar le parece que es buena es una buena medida

no es creíble por qué cree usted que hace dos años el ochenta por ciento de las inversiones extranjeras en españa y en el país vasco pasaban

por qué cree usted que era porque pagaban más impuestos porque las condiciones laborales eran peores por qué cree usted que porque es que los sindicatos allí les iban a hacer la vida imposible por qué cree que era

hágaselo mirar no me venga diciendo que ustedes apuestan mucho por las empresas

se han encargado de espantar de este país durante muchos años a cientos de empresas por no decir cerrar cerrar otros cientos de empresas y ahora nos viene muy preocupado por las empresas vascas qué si se van o se quedan le tendré que decirle que no es creíble que usted ha venido aquí a hacernos el discurso

son contra las empresas todas las medidas son para que se queden aquí todas las medidas son para que no inviertan aquí todas sus propuestas fiscales económicas de infraestructuras es para que no estén es para que no estén

le vende usted mucho esto pues me parece muy bien nosotros no se lo compramos eskerrik asko damborenea jauna eztabaida

sí gracias presidenta buenos días teniendo

los socialistas vascos hemos votado en contra de la toma en consideración de la proposición de ley

para regular la determinación de las obligaciones y limitaciones de las empresas que perciben ayudas públicas

no para evitar ningún debate sino por dos razones fundamentales primero porque compartimos con el gobierno que las limitaciones y medidas

en los reglamentos europeos son medidas que son adecuadas sin duda mejorables pero por el momento adecuadas

los cambios de localización de tareas y de propiedad y la utilización de tecnologías de la información hacen que la competitividad empresarial adquiera también

con mercados abiertos logística y tecnologías en constantes proceso de innovación y una competencia

por eso en este contexto la empresa debe ser capaz de satisfacer las necesidades de sus clientes de manera más eficaz que sus competidoras y proporcionar bienes y servicios

es necesario llevar a cabo nuevas estrategias empresariales que doten al producto de un valor añadido estrategias basadas en la calidad

con la finalidad de generar personal más especializado y más capacitado para los sectores de mayor intensidad tecnológica y el propósito de la deslocalización generalmente

que ya no resultan competitivos en la ubicación de origen y la labor del gobierno vasco

una localización empresarial atractiva evitar competir con estrategias basadas en los costes laborales y al igual que las empresas los países y las regiones tenemos que resultar competitivos la elección de la localización de una inversión es un asunto para una empresa de carácter estratégico que obliga a considerar numerosos

entre ellos también las ayudas o los incentivos públicos y en europa los incentivos están ordenados en diferentes reglamentos

y evitar la inflación de ayudas entre diferentes estados y regiones y el gobierno vasco en su política de incentivos para la localización empresarial en euskadi

de subvenciones que recogen medidas de apoyo y medidas también en contra de esa deslocalización empresarial que nos trae hoy aquí el asunto de la proposición de ley y se hace en el marco de la normativa europea y se establece también en esa normativa que tenemos el reintegro de las ayudas cuando estas no obedecen a los objetivos para los que se habían planteado

es porque ya está regulado este asunto de las subvenciones y de las ayudas para evitar la deslocalización de empresas como se decía antes a través de la normativa

pública vasca y también en diferentes órdenes y normativas que se van sacando o utilizando por parte de los diversos departamentos entre ellos el de desarrollo económico y competitividad y por ello

sean normativas y sean programas de ayudas para incentivos para la localización de esas empresas en euskadi pero que además cuentan también con una normativa específica

si estas no cumplen con el objetivo de la localización y se produce la deslocalización de empresas por lo tanto esperamos que el proyecto de ley de subvenciones

si logra consensuar una mayoría más amplia que la que en estos momentos existe con la actual normativa

y se ha mostrado a favor y hemos votado a favor de la tramitación de esta proposición de ley porque a diferencia de lo que se ha dicho aquí creemos que el gobierno vasco a día de hoy no tiene ninguna herramienta suficiente para hacer frente a la deslocalización de las empresas entre otras cosas no tiene

para declarar cuándo se produce una deslocalización o no

de esta proposición de ley que posiblemente era mejorable seguro que era mejorable pero era a diferencia de lo que ha dicho el gobierno es totalmente legal es totalmente pertinente y es totalmente necesaria necesaria sí pero insuficiente también

porque hace referencia a las subvenciones pero no hace referencia a las ayudas financieras no hace referencia a las participaciones industriales que también tienen las administraciones públicas y entre otras cosas

las empresas posiblemente van a seguir deslocalizándose igual igual general electric pagó y devolvió todas las ayudas que había obtenido antes de deslocalizarse

posiblemente nos va a venir cuando tengamos un nuevo modelo de empresa en un nuevo modelo de economía un modelo de empresa basado

o en cualquier modelo donde quienes son dueños y dueñas de la empresa no tengan la tentación de irse a otro lado porque lo he dicho una y mil veces

el capital no tiene arraigo el capital solo tiene intereses

y para presionar a la baja los salarios y las condiciones laborales en origen

del capitalista pero en perjuicio de la economía de la economía del país y de la economía de las familias que pierden el poder adquisitivo industria que se va es industria pérdida diga lo que diga el gobierno

por eso yo creo que aquí lo importante no era tanto la proposición de ley ni su contenido que posiblemente en una tramitación hubiera sido mejorado sino la voluntad la voluntad que muestran los grupos a la hora de votar

es muy diferente a la que se muestra cuando la proposición es no de ley

el asunto es lo que votamos cuando lo que votamos es una ley algo para cumplirse y ahí es donde empiezan los problemas y por eso nuestro grupo ha mostrado el mismo compromiso y la misma coherencia cuando se vota una proposición no de ley

de ley y es una pena que esa misma coherencia no se vea en algunos grupos
que se dicen progresistas y de izquierdas gracias eskerrik asko becerra jauna euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

francamente interesado en el mundo de la empresa interesados para que no se vayan de euskadi ni las empresas y supongo que ni los empresarios

para visitar empresas de diferentes ámbitos y eh bildu se negó alegando que venía de una organización de empresarios cuando hoy

que hay que trabajar para evitar la deslocalización hay que lograr que las empresas no se vayan de euskadi porque compartirán con nosotros las empresas son la raíz

en el país por tanto estamos con ustedes en que hay que trabajar para tener más empresas y para que las que con nosotros se queden se sientan cómodas

se debe en la mayoría de los casos a buscar una mayor competitividad la cual se puede lograr de muy diferentes maneras hay una que es la de las razones salariales

aunque también pudiera ser que una empresa encuentre regiones y países con una estructura de apoyo más favorable un ecosistema organizativo mejor logístico tecnológico e institucional que les permita mayor estabilidad y competitividad esa variable

es contra la que debemos luchar con más esfuerzo lo que significa que en euskadi en ese ámbito es en el que debemos desarrollarnos en el ser un país acogedor para empresas competitivas con alto grado de desarrollo tecnológico logística avanzada y un entramado institucional insisto

eso no quiere decir que con preocuparnos de crear internamente un modelo de desarrollo económico y de apoyo a las empresas óptimo no debamos preocuparnos porque a pesar de todo habrá empresas

ahora bien si al trasladar ustedes ese proyecto de ley quieren hacer pensar a esta cámara y a quienes están más allá de esta cámara que esto es una novedad valiente e inteligente porque no se hace ese trabajo desde las instituciones en eso están equivocadísimos ya desde el ámbito comunitario

el reglamento trece barra dos mil trece referido a la totalidad a la totalidad de fondos de la ue

de devolución de ayudas en caso de deslocalización y aquí en euskadi

ningún artículo en cada convocatoria de ayudas para remarcar la necesidad de su devolución solo como ejemplos

en su orden de convocatoria del dos mil dieciocho la última en su artículo dieciocho sobre incumplimientos señala que esos incumplimientos significarán la devolución de las ayudas

entendiendo como tal el traslado fuera de la comunidad autónoma del país vasco de todo o parte de la producción de la beneficiaria el programa gauzatu en su orden de convocatoria de dos mil dieciocho la última

la deslocalización de las inversiones financiadas por este programa supondrán la incoación del oportuno expediente de incumplimiento y reintegro de las ayudas recibidas y así

que el gobierno vasco tiene claro que las empresas que se van de euskadi que se deslocalizan

y eso en el gobierno se tiene claro y no hace falta que eh bildu venga a proponer una ley para que parezca que el gobierno no se aplica en el principio de

un clima de apoyo a la empresa en euskadi que haga no solo que no se deslocalicen sino que procuremos que otras se deslocalicen de sus territorios para venir a euskadi

y una oportunidad fiable para desarrollar sus empresas aunque ustedes luego nos las visiten cuando inviten a los parlamentarios a hacerlo por último

al hilo de su proposición sino que al comienzo de la legislatura enviaron a este parlamento un calendario legislativo en el que se incluía la ley de subvenciones ley

si el gobierno ya lo practica si el gobierno ya tenía previsto una reafirmación del tema

a qué adelantarse a su texto si tendrán la oportunidad de trabajar el proyecto mediante enmiendas si la devolución de las ayudas a empresas deslocalizadas está regulada en la normativa actual

contemplando también las devoluciones por diferentes motivos entre los que estaría la deslocalización no tiene sentido tramitar una ley que quiere prever lo ya previsto

desde euskal herria bildu presentamos esta moción consecuencia de una interpelación de una interpelación de hace quince días pero bueno también presentamos esta moción como consecuencia de una situación

y entendemos que tomar medidas efectivas es más urgente que nunca porque no vamos a permitir lo decíamos entonces también

según donde vivan y trabajen el despoblamiento se está convirtiendo en un problema pero esto no lo digo yo

sus palabras hace unas semanas fueron como poco curiosas en cuanto a la imagen que yo proyectaba decía que yo proyectaba una imagen catastrofista

a cualquier gobierno le puede interesar que la oposición proyecte una imagen tremendista pero no es el caso y no es mi caso quiero mostrar que mi intención es sumar es proponer construir es generar sinergias porque estamos obligados a eso además pero superando maneras partidistas de parchear problemas los problemas reales que tienen las personas que viven en el mundo rural

somos realistas porque la realidad muchas veces nos coloca nos recoloca y nos demuestra la ineficacia de muchas decisiones hoy traemos datos datos reales y datos concretos y datos adaptados a la realidad el señor urkullu nos dijo que en la comunidad autónoma vasca había trescientos habitantes por kilómetro cuadrado sí no estaba mintiendo les décimos que en araba hay ciento siete habitantes por kilómetro cuadrado sí tampoco mentimos

que araba sin gasteiz tiene veintiocho habitantes por kilómetro cuadrado podríamos padecer

que podríamos compararnos perfectamente esta macrocefalia que hace gasteiz bueno pues se supone que el territorio poco a poco se vaya vaciando

todos los servicios y las comodidades todas están en gasteiz así que el efecto llamada

es cada vez mayor yo diría incluso que puede ser trágico porque la gente que se marcha del medio rural es muy difícil que vuelva

la situación del medio rural en el tablero de juego un tablero de juego donde moviendo peones sin adelantarlos pues no podemos ganar la partida un tablero de juego donde nos jugamos el país no solamente el país que tenemos sino el país que vamos a dejar a nuestras próximas generaciones

se debe decidir qué país qué medio rural también qué medio urbano pero qué territorio queremos

no nos importa euskal herria bildu cree que este es un tema preocupante y por eso lo llevamos allá donde entendemos que se pueden tomar medidas y decisiones hace un año se presentaba una moción en juntas generales de araba y bueno se salió por unanimidad se votó y allí hubo un acuerdo bastante

desde euskal herria bildu lo he dicho y repito creemos que en un territorio equilibrado

en ese medio rural porque la vida es necesaria pero es que nos lo creemos y por eso entendemos que un pacto de país

es absolutamente imprescindible creemos en el territorio vivo vale pero no creemos en la teoría creemos que la practica debe ponerse por delante en las personas en los pueblos y en un sector primario con futuro que sea el que garantice pues no solamente que haya empleo sino que la gestión de los montes y del territorio

para nosotros no solamente esto es una oferta era una oferta la moción de hoy sino que también es un sueño además y además es que no es euskal herria bildu quien solamente se lo cree y lo reivindica el pasado quince de mayo día grande en muchos pueblos día de san isidro labrador como se le llama pues agentes del medio rural

al teléfono en la que reivindicaban a través de un video cómo estaban las cosas los problemas que sufren diariamente las personas que viven en el medio rural

y no es para menos además es que en esta campaña del quince de mayo

sorprende como poco sorprende que el lema sea estamos aquí es que parece que no estamos mirando hacia allá es que hace falta decir que estamos aquí así a primera vista sorprende en este

estaban los agentes que realmente militan en el medio rural este lema el que estamos aquíhemen gaude yo creo que nos debe recolocar nos debe plantearnos y además nos debe plantear a quienes debatimos las políticas públicas y además nos obliga a mirar un poco más allá

nuestra preocupación por las zonas rurales no es tremendismo lo repito es real y además no tenemos más que mirar hacia fuera y escuchar no es más que eso

en la centralidad política intentar sensibilizar a quien tiene en sus manos la capacidad de acción así como

ideas alternativas pero como país para hacerle frente somos conscientes

una es asumirlo damos por hecho que el medio rural se vacía y lo vemos pasar y esperamos es verdad que esa parte es cómoda la segunda es seguir impulsando seguir haciendo que algo cambie que poco cambie para que nada cambie bueno

y la última es plantear un pacto de país por encima de partidismos por encima de votos y por encima de datos macroeconómicos

tampoco lo han tenido por eso la necesidad de entendimiento de coordinación y de consenso que era yo lo que esperaba que hoy tuviesemos encima de la mesa cualquiera de estas tres opciones nos obliga a movernos

pero nos obliga a garantizar también que tenga éxito porque si no esto se vacía y nosotros mientras estaremos aquí y seguiremos aquí debatiendo las acciones públicas desde hace cuarenta años desde luego no han servido para frenar el éxodo rural

es que me podría atrever a decir que han fracasado incluso veinte años después seguimos hablando de cómo revitalizar los pueblos de cómo creamos empleo de cómo mantenemos las escuelas de cómo impulsamos

muchas de estas acciones de desarrollo rural han fracasado no han sido verdaderas políticas públicas ni con agentes diversos que cuentan efectivamente con recursos diversos y los ponen encima de la mesa para desarrollar acciones que dan respuesta a necesidades reales

ha sido más bien el surgimiento de numerosos órganos de numerosos organismos y entidades de distinto carácter que todos conocemos que han gestionado recursos públicos sí efectivamente para el medio rural

entiendo además que queremos resultados y que queremos lo mejor siempre en esta casa siempre se quiere lo mejor para la ciudadanía entonces en este caso nunca mejor dicho queremos lo mejor para la gente que vive en las zonas de montaña y para quienes vivir en el medio rural segunda división para eso necesitamos políticas en mayúsculas no planes ni acciones necesitamos políticas

interdepartamentales al servicio del medio rural esto significa ruralizar las políticas públicas

pública de la administración políticas de desarrollo rural que deben ponerse en marcha y desde luego que deben valorarse se debe hacer una foto sin autocomplacencia por favor una foto real un diagnóstico estas políticas que tendrán que ser compartidas con las personas que viven allá en el medio rural y si no nos las estaremos inventando si no lo hacemos así

el tema de la igualdad por todos los departamentos pues el tema de la parte rural

como parte intrínseca en todas las medidas áreas y departamentos del gobierno desde luego políticas endógenas que tienen que

quien de verdad sufre y ve la necesidad porque desde aquí muchas veces

y políticas que ofrezcan oportunidades no solamente de desarrollo económico y empleo sino también oportunidades personales

tiene derecho a un bienestar y desde luego poniendo por delante el arraigo así que para que todo esto se dé necesitamos garantizar incluso diría yo que repartir responsabilidades derechos y deberes un poco a todos a la administración como parte de responsabilidad que tiene porque necesita una perspectiva de pasado de lo que ha pasado hasta aquí y por qué estamos hoy hablando hoy aquí en el dos mil diecinueve sobre esto y sobre todo de futuro necesitamos una foto real pero una foto que no sea en blanco y negro una foto cierta una administración que tendrá que ir poniendo estrategias y directrices de hacia dónde vamos

una administración que tenga que garantizar el diálogo y sobre todo la escucha y bueno la flexibilización de normativas que no solamente le corresponde a la administración en sí sino también a la parte técnica de la administración

empatizar que tiene que sensibilizarse con lo que está pasando

de que el medio rural y las personas que allá viven pues viven en inferioridad de condiciones a la administración cómo no pedirle un presupuesto garantizado sí pero también

también tiene esa parte de derecho de responsabilidad y de deber pero le pedimos sobre todo corresponsabilidad porque el territorio no es solo de las personas que viven allá

es un territorio común entender que el problema de la despoblación es un problema compartido y desde luego todas las partes tendrán que funcionar de manera proactiva para la recuperación y verlo además como una oportunidad como una apertura de oportunidades incluso yo diría para articular puentes para que se pueda facilitar la vuelta a los pueblos o sea que el reto sería no solamente que no se despueblen sino

y bueno me queda el sector primario al que asumir unas responsabilidades y unos derechos hay que abrirle posibilidades hay que garantizar su supervivencia sí lo que no sabemos muy bien es la fórmula porque de hecho de momento no estamos garantizando no hemos acertado se le exige la gestión sostenible del territorio sí se le exige transparencia

vamos a plantear también la defensa de la tierra como algo prioritario y sobre todo a la administración y a la sector

la fórmula de hasta ahora no ha valido y cada vez la tierra está en manos de menos personas y bajo multinacionales algo que nos lleva del precipicio hacia abajo

entendíamos que compartida y los tres puntos eran muy sencillos y además fáciles de acordar sobre todo porque venían acordados ya previamente de araba y era casi casi algo que estaba hecho

en la primera parte planteábamos que el gobierno y planteamos que el gobierno cumpla la moción de juntas generales de araba y ponga recursos en sus departamentos

la segunda parte planteamos que tiene que ser una estrategia de país por encima de los partidos políticos para revitalizar los pueblos y para repoblarlos

veinte años creemos que ya es hora de que llegue de ponerla encima de la mesa incluso de debatirla no solamente actualizarla sino que hay que debatirla entre todos

porque en esta casa si todo puede empeorar creo que empeora una sorpresa ayer cuando yo en un buen intento de texto transado porque lo acabo de decir era intención transar hacer algo en conjunto porque creo que es un tema además que tiene que ser

partido popular partido nacionalista vasco y partido socialista ya tenían un texto cerrado por cierto lo acabo de leer hoy a las nueve y media de la mañana bueno hubiera agradecido

y trabajan en los pueblos decepción desde luego en esta supuesta negociación un juego diría que poco elegante

desde luego nuestra propuesta y acabamos de transar ahora por la mañana con podemos porque está basada en la inicial porque queríamos traer el despoblamiento aquí porque creemos que la posterior ha sido hablar de la pac de digitalización y hacer algo que el gobierno tiene que hacer que es presentar los anteproyectos de ley nada más o sea que

desde euskal herria bildu vamos a seguir trabajando para revitalizar repoblar los pueblos para asegurar que el sector primario sea estratégico en el territorio

entendemos que hay que acordar el país que queremos entre todos y todas sino esto no tiene ningún sentido

queremos personas vivas trabajando y viviendo en el medio rural tan sencillo como eso bukatzeko jendeak hirietara jotzen du eta landa eremuak egoera

voy acabar con una reflexión de un agricultor que es de la zona de campos de tierra de campos de palencia

que hace una reflexión absolutamente impresionante y les invitaría a leerla

que nos plantea y nos decía que este primer reto un reto incluso que se lo traduce a la parte personal a ver si seriamos capaces de poner en práctica un proceso migratorio inverso de la ciudad al campo yo creo que el objetivo y el reto de esta cámara hoy más allá de hablar de despoblamiento más allá de hablar de políticas tenía que ponerse ese reto vamos a ver si somos capaces de repoblar

la iniciativa de traer aquí esta proposición no de ley

también es un problema de euskadi se está hablando de la españa vaciada pero también hay una euskadi vaciada o una euskadi en vías de vaciarse

y se nos hará ver que el principal problema es el envejecimiento de la población pero resulta que el envejecimiento de la población tiene un efecto desigual no afecta igual a todos los municipios y en lo que sí hay un acuerdo hay un acuerdo hay un consenso entre los expertos y expertas en materia demográfica es que las conductas demográficas que hacen que la gente se vaya de un pueblo a una ciudad y no vuelva

la calidad de vida la segunda la estabilidad económica y la tercera la compatibilidad o la posibilidad de compatibilizar la vida laboral y familiar sí esas tres condiciones haya envejecimiento o no haya envejecimiento

y con esas tres condiciones no emigra sin más horrexegatik baldintza horiek hiru baldintza horiek

porque evidentemente si no compartimos un diagnóstico sobre las causas de la despoblación difícilmente vamos a compartir las soluciones que son necesarias y nuestro grupo es crítico porque después de treinta o cuarenta años de supuesta lucha

en euskadi en araba pero también en españa si una conclusión tiene nuestro grupo es que no basta con dar dinero no basta con hacer carreteras no basta con hacer llegar el progreso el supuesto progreso primero a la televisión a los pueblos había que hacer llegar la televisión luego la telefonía móvil

no basta con eso para frenar la despoblación y en españa después de aplicarse esas políticas

habitantes por hora cinco habitantes por hora y por lo tanto es necesario un enfoque transversal y de ahí la importancia

y porque además le aplicaba un enfoque interinstitucional todas las instituciones tienen que colaborar esto no es cuestión solo de las diputaciones ni de los concejos ni de los municipios también es del gobierno vasco

de poblamiento rural porque es necesario que todas las instituciones remen pero también es necesario el enfoque participativo y aquí

la encuesta que hizo la asociación de concejos de araba las opiniones de personas expertas y también las experiencias exitosas que las hay por el mundo

los vascos y vascas no somos los mejores en todo no lo inventamos todo y cuando escuchamos a la población y vemos las encuestas

que lo que se está pidiendo no es más dinero no es más carreteras

públicos servicios públicos de calidad están pidiendo vivienda porque tienen la competencia de las viviendas residenciales porque muchos municipios que se están despoblando

están pidiendo educación pero no solo educación primaria están pidiendo educación secundaria también o escuelas unitarias porque cuando los jóvenes los y las jóvenes se tienen que ir a la secundaria no vuelven al pueblo ya

son cada vez más porque se van los jóvenes y las jóvenes y están pidiendo una cosa muy curiosa transporte público

no queremos depender del coche privado no nos hagan más carreteras por favor dadnos transporte público

qué curioso lo contrario a lo que se ha propuesto históricamente en este país y cuando se lee las conclusiones de los concejos de la asociación de concejos de araba y se plantean las líneas estratégicas generales para un plan de poblamiento

pone el acento en potenciar proyectos comunitarios en crear comunidad a través de la mejora de las relaciones vecinales en fomentar el asociacionismo y en potenciar los concejos es decir

la administración porque el factor diferencial que hace que en una misma comarca haya municipios que se despueblan y otros que no es la vida comunitaria es considerar que tu pueblo es tu comunidad y a eso no se hace referencia en ningún sitio por eso llama la atención que cuando uno lee

opiniones de personas expertas y voy a traer solamente dos para terminar mi intervención una es del catedrático de geografía humana de la universidad de cantabria pedro reques

las medidas no están dando los resultados esperados por no estar adecuados a las necesidades reales de esos lugares es decir

pero además cuando se analiza un caso de éxito que ha sido

la repoblación o la lucha contra la despoblación de las tierras altas en escocia que han recuperado un veintidós por ciento de población y uno ve las medidas que han puesto en marcha

que en lo que se basan fundamentalmente es en la dotación de equipamientos en la oferta de vivienda asequible y de calidad en la disponibilidad de servicios en la conectividad y las comunicaciones también

y en el emprendimiento y en los trabajadores especializados no solo en el empleo rural ligado al sector primario tenemos además más cerca otro experto eduardo malagón profesor de la upv y evaluador de políticas de desarrollo rural que nos habla de la experiencia de suecia

hacían cola para solicitar su cupo de inmigrantes porque sabían que con ellos podían rejuvenecer demográficamente sus municipios

servicios públicos por lo tanto señores y señoras sabemos lo que funciona y sabemos lo que no funciona y lo que hay que hacer es tomar

gracias señora presidenta buenos días señor consejero señorías eh bildu nos trae

a esta cámara sobre el tema de la despoblación nos decía en la interpelación la españa vacía

con la situación que algunas zonas especialmente en el interior de españa

el vaciado de su población no tiene nada que ver el espacio

y el territorio del país vasco nos sorprende que utilice este argumento a la españa vacía nos traiga el problema de españa a esta cámara no nos parece mal

que nos traiga el problema de españa a esta cámara nos parece muy importante por centrarnos en la población del país vasco a día de hoy

son inmigrantes llegados en los últimos cinco años principalmente una población similar a la que había en el país vasco

en el año mil novecientos setenta y cinco empezó a subir la población llegó al año mil novecientos ochenta y tres con

dos millónes ciento cuarenta y ocho mil pero hubo una crisis industrial y

y nos hemos ido moviendo en esa horquilla año tras año la verdad es que

cómo va a responder la población inmigrante pero la población del país vasco

los datos es que para el dos mil treinta y uno pues habremos bajado en torno a casi

hacía referencia a la ley de desarrollo rural de hace veintiuno años de abril de mil novecientos noventa y ocho y también ya ahí se hablaba de despoblación

estructural una situación insostenible y que hay que dar una solución porque decía que el medio rural a día de hoy no ofrece oportunidades dice que no ofrece oportunidades de empleo no ofrece oportunidades de trabajo y cada vez es más complicado mantenerse por sí mismo

hace referencia a álava porque bizkaia y gipuzkoa

un periurbano continuado que nada tiene que ver con álava eso es verdad nosotros tenemos los trescientos treinta y cinco concejos que tienen veinticinco mil personas veinticinco mil quinientos aproximadamente lo que da una media de setenta y tres

que están entre cien y treinta y luego tenemos ayuntamientos cincuenta y uno ayuntamientos pero es que solo hay

por lo tanto tenemos muchas zonas diseminadas en poco espacio

es la que es la estructura es singular es singular hay que decirlo

resiste el envite porque tiene un producto estrella que es el vino un producto estrella que genera una producción

que tiene un futuro halagüeño

un sector de servicios en torno a esta actividad que es muy potente y de alguna manera aquí se mantiene y en el resto

la actividad agrícola y ganadera que se da en el resto de álava ha sufrido una

se ha aumentado la producción y la seguridad alimentaria y se ha agilizado el trabajo de los agricultores y de los ganaderos se ha facilitado de manera que las explotaciones aumentan en volumen pero necesitan mucha menos mano de obra y la que necesitan es cada vez especializada podríamos decir que esto

no vivir a pie de explotación y en algunos casos se opta por fijar la residencia en los núcleos próximos de mayor población en lo que realmente sucede es

pues bueno un desplazamiento de la poblacion hacía núcleos de mayor volumen porque efectivamente

pequeño el concejo pequeño nos hablaba usted de cómo se reparte nos hablaba de desequilibrio territorial en álava y nos decía que un treinta y dos por ciento es espacio agrícola

y un cinco por ciento es espacio urbano y lo hablaba como un desequilibrio

capacidad nos da capacidad para ampliar explotaciones ganaderas producimos solo el treinta por ciento de carne que consumimos por lo tanto creo que tenemos espacio para poder ampliar las producciones ganaderas pero no se hace

hemos perdido la pasión cómo hacer más rentables las explotaciones nos empeñamos en llegar ahí o

este espacio nos da capacidad para actividades de transformación de productos agrarios pero no lo hacemos estamos como estábamos tenemos muy baja

actividades de ocio culturales turísticas ligadas a la naturaleza poquito desde el grupo popular hemos insistido en esta cámara por activa y por pasiva la necesidad de impulsar actividades económicas complementarias a la actividad agrícola y ganadera

las políticas de la pac facilitan esto pero no lo hemos hecho no lo hacemos por lo tanto

también se pueden implantar nuevas producciones fáciles de llevar y que pueden ser complementarias veía hace unos días un documental la producción de espirulina que es fácil y sencilla altamente sostenible que es asequible para pero tampoco nos preocupamos por nuevas producciones que puedan ser o si nos preocupamos por qué no surgen

altamente demandado altamente bien pagado por lo tanto

yo quiero repetir tenemos ganas de generar actividades económicas en el medio rural o

y ya vale me conformo con eso porque a veces también pasa eso nosotros desde el grupo popular la iniciativa que presentaba la señora

el parlamento vasco inste a la diputación a que cumpla un acuerdo que se ha aprobado en sus juntas

eso es lo que nos viene un acuerdo que se ha cumplido allí que nosotros le instemos a que lo cumpla creo que el parlamento esta cámara

sus líneas de trabajo para poder impulsar los pdrs

a las realidades que tiene una política agraria común donde puede aplicar medidas

en el ámbito rural y por lo tanto nosotros la enmienda que hemos llegado a acuerdo que nos parece que hace referencia

y reivindicaciones de las zonas rurales a defender que la nueva pac proponga un modelo de discriminación positiva para proyectos y medidas de desarrollo rural

también instamos al gobierno vasco a que junto con las diputaciones forales sigan impulsando

fomentar actividades económicas y oportunidades de empleo y futuro en nuestros entornos y efectivamente insistimos en que hay que traer la ley de desarrollo rural

y para ello consideramos imprescindible diseñar programas específicos que fomenten por un lado el emprendimiento la creación de empleo

el empleo la vivienda y el sector servicios nos hablaba el señor becerra del transporte público

y yo veo pasar el autobús de transporte público vacío claro que pedimos pero luego

y cuando hay poca población es muy difícil hacer en algunos casos hay transporte a la demanda y prácticamente no se utiliza saben lo que hacen en el norte de escocia saben lo que hacen no amplían las carreteras no por el entorno del lago ness te tienes que parar cuando viene un coche de frente te

no no porque queremos que el que venga se quede y no se mueva así de claro o sea se mueva lo menos posible no

es su concepto pero probablemente el escocés que ha ido allí

tenemos nosotros nosotros queremos estar en el medio rural y en el medio urbano

ágil y queremos todo lo uno y lo otro y eso es más complicado no renunciamos a nada lo queremos todo que me parece bien pero eso es complicado entonces tener un transporte sostenible en el ámbito rural es prácticamente

señorías nosotros creo que hemos hecho una iniciativa interesante vendrá aprobar los planes de desarrollo rural los planes locales para que luego se incorporen de la comunidad autónoma y creo que ahí se pueden meter las medidas es una de las vías fundamentales porque lo que ustedes aprobaron en juntas de álava va en esa línea

presidenta señorías estamos de acuerdo compartimos que

y muy recientemente tuvimos la ocasión de contar aquí con expertos europeos

está la despoblación está la concentración cada vez más

en núcleos urbanos y obviamente eso tiene una afección directa a todas las personas a unas les afecta en su modo de vida a las que viven en el mundo rural pero al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas nos afecta en infinidad de cosas

potente es bueno para luchar contra el cambio climático es bueno para el medioambiente

para evitar incendios para evitar plagas para evitar desequilibrios de la naturaleza

es un problema que ya el conjunto del planeta lo tiene situado en un horizonte y muy especialmente la unión europea que sabe

que si no se corrige va a ir en aumento a la concentración de poblaciones

en el abandono del medio rural sino una concentración

en las ciudades de más tamaño en relación también a las ciudades de menos tamaño porque también entre las ciudades más pequeñas y las ciudades más grandes una diferencia de servicios de oportunidades de calidad de vida etcétera estamos de acuerdo con que el envejecimiento de las poblaciones

evidentes también en la falta de relevo generacional en las actividades rurales es necesario abordar ese asunto

acierto del que se está haciendo efectivamente hay que apostar por fijar poblaciones en el mundo rural y quizás por qué no

de las ciudades que piensen si se dan las condiciones que en el mundo rural puede tener una mejor calidad de vida estamos de acuerdo por tanto en la necesidad de seguir trabajando en el área del empleo la educación la sanidad el transporte

tecnológicas el ocio el patrimonio cultural la vivienda y sobre eso muy recientemente en esta misma cámara se volcaron

a la interpelación que ha motivado hoy esta moción respondió con muchos datos

las ayudas europeas como en el impulso de las

centros de salud se dieron datos sobre colegios públicos se dieron datos de inversión en infraestructuras en servicios bueno yo creo que hubo

un desarrollo en relación a esa interpelación de datos

a mí me parece que sería también razonable que no se planteara este asunto como un asunto apocalíptico como

como todo mal y solamente a partir de ahora puede ir todo bien si se hacen

la mejor forma de poder evitar eso que se planteaba aquí de que aquí no hay que incluir actitudes partidarias sino que hay que ir todos a una

hombre la mejor forma de hacerlo es estableciendo en principio diagnósticos que sean concretos que no estén plagados de generalidades

de qué se necesita que efectivamente es distinto

es distinto en poblaciones de alta montaña que de la llanada es distinto en poblaciones de un determinado tamaño que en otras que tengan

una diversidad de situaciones que no se pueden englobar en que todo está mal yo creo que parte del enfoque que se ha pretendido

de alguna forma produce un cierto rechazo al acuerdo porque genera una visión tan apocalíptica que

en una visión mucho más razonada mucho más cuantificada mucho menos titularizada

eslóganes pues probablemente vamos a poder avanzar esa idea en ese pacto y

al conjunto de las fuerzas políticas como aquí se reclamaban pero yo quiero detenerme solamente en un aspecto para finalizar esta intervención

parece más bien al contrario que es el mayor que es el más importante y es que el parlamento vasco

que se dedique a la poesía la poesía en todo caso cuando se hace hay que llevarla a la prosa la prosa hay que llevarla a los números y los números a las ejecuciones y eso significa que entre diciembre y diciembre

estar una cámara sin presupuestos no puede estar un gobierno sin presupuestos no es posible querer lo mejor para el mundo mundial y negar la herramienta fundamental y principal para poder hacer esas políticas y yo creo que aquí es donde falta esa capacidad de acuerdo valentía ese asumir riesgos para que hoy pudiéramos disponer de herramientas políticas que en el mundo rural también estuvieran incidiendo y estuvieran influyendo en todas esas áreas sectoriales de las que aquí se plantean la política

se hace a partir de la aprobación de los presupuestos hemos tenido una oportunidad magnífica para poder llevarlos adelante pero

no se si el miedo escénico el tembleque de la rivalidad o qué otro aspecto ha impedido que aquí hubiera una mayoría suficiente para poder abordar un presupuesto que habría atendido a muchas de las cosas

menos poesía más prosa más números es decir presupuestos que sean ejecutables

entre presupuesto y presupuesto aquí cada uno viene a contar su historia viene a contar su libro pero luego no hay instrumentos para poder llevarlo adelante

no se trata de predicar se trata de dar trigo y nunca mejor dicho

eguerdi on guztioi si de lo que se trataba con esta moción era intentar mostrar que los proponentes se preocupan del desarrollo rural y los demás no

y debatir del tema pues por ahí el camino nos parece bastante más interesante no obstante un par de apreciaciones previas

en la interpelación origen de esta moción se traía a colación como una derivada del debate que se creó en tierras españolas sobre la españa vacía y así

durante la campaña para el congreso y el senado la realidad rural vasca y la españa vaciada

ni en lo que de abandono supone ni en los esfuerzos que las administraciones hacen ni en su misma concepción política son por decirlo de alguna manera sintética dos mundos contrapuestos la segunda apreciación es que no se puede venir con una moción

ni se puede venir a pedir a este parlamento que les pida a las diputaciones de bizkaia y gipuzkoa que se apliquen en lo aprobado por las juntas generales de araba este parlamento

elegida para impulsar la labor del gobierno vasco y para controlar su acción no está para decirles a las diputaciones forales lo que deben o no deben hacer que para eso están

ya que ostenta la doble responsabilidad de parlamentaria y de juntera más cuando la moción de las juntas generales de araba a la que se refiere data de hace un año en ese año

en ese año no se les ha ocurrido a usted y a sus grupos junteros llevar el asunto a las juntas generales correspondientes en un año no han reverberado aquel debate en otros en las juntas generales como el de hoy en este parlamento si aquella propuesta se aprobó por unanimidad de las juntas generales de araba parecería lógico

adaptado a cada institución pero no mimetizado porque en este parlamento no deberíamos por ejemplo aprobar que la diputación de araba cree un foro institucional para abordar el desarrollo rural lo mismo que no parece lo mejor aprobar en este parlamento una propuesta que se refiere al gobierno y que fue aprobada por las juntas generales de araba que dice

respecto a las necesidades y reivindicaciones de las zonas rurales alavesas claro podríamos hacerlo pero supongo que refiriéndonos a todo el entorno rural vasco incluyendo a gipuzkoa y bizkaia aunque todos sabemos que

y corregido en la enmienda que habíamos presentado merece la pena hacer un breve recorrido sobre el mundo rural vasco como les he dicho al principio para empezar

y desde luego muy alejada de la españa vacía no obstante la hay aunque el aislamiento de un pueblo de las urbes

pues si bien hay pueblos por ejemplo en rumania unión europea o en las highlands escocesas alejados a distancias

donde puede concentrarse ciertos servicios públicos

esa sería mínima en los casos más extremos y el araba es solo

esas distancias en el caso de euskadi son distancias muy bien comunicadas eso no quiere decir que no hay ruralidad la hay respecto a los servicios a que los servicios son más fácilmente accesibles en pueblos grandes y hay un porcentaje de personas

lo que hay que considerar aunque se trate insisto de una ruralidad relativa y no será porque el gobierno vasco y las diputaciones forales no se hayan empleado a fondo en el asunto y aquí sí aquí voy a citar expresamente a la diputación foral de araba que el tema lo tiene en su frontispicio de actuación política porque sabe que la materia de desarrollo rural es transcendental en este territorio el gobierno vasco solo desde la viceconsejería de agricultura solo de esa viceconsejería en los últimos tres años ha procedido desde todos los programas subvencionados que tiene

leader y el programa de financiación de eventos sociales

ha gastado más de cuarenta y tres millónes de euros esa cantidad

pero es que además financia proyectos que deben encajar con la programación de prioridades que establece cada asociación de desarrollo rural

ayuntamientos juntas administrativas agentes sociales culturales sindicatos agrarios

son programas elaborados participativamente y en los que cada comarca decide cuáles son las prioridades para sus ciudadanos en cada periodo de programación

participación vivir en el mundo rural es cuando uno nace una obligación pero a medida que la vida avanza puede convertirse en un acto voluntario y en euskadi no es desde luego una heroicidad lo que no quiere decir que esté exento de un cierto mérito derivado de aceptar vivir con una cierta desigualdad al menos con lo que respecta a una asimetría en la proximidad de servicios públicos con los que la administración

lo cual siendo en cierta medida injusto tiene una cierta lógica en lo que supone el reparto de los recursos públicos

una medida objetiva de la justicia al menos en lo que respecta a los servicios públicos ningún habitante del mundo rural de euskadi carece de la atención social sanitaria y educativa que recibe un habitante de la urbe es cierto

el habitante del mundo rural tanto para acceder a un servicio especializado sanitario o a una escuela tenga que desplazarse distancias algo superiores a las que deberá recorrer el urbanito pero más allá de esa asimetría

y todo ello ha sido posible gracias a una actuación de las administraciones públicas que han ido escuchando a los ciudadanos del mundo rural para atenderlos en la medida de sus posibilidades presupuestarias y por cierto por cierto siempre atendiendo a unas ratios de servicio por habitantes bastantes menores en la zonas rurales pues de otra manera no se entenderían

como no se entendería y por mucho que usted señora lópez de arroyabe ninguneara el tema en la interpelación de hace un mes al lehendakari lea el acta y verá

el esfuerzo que está haciendo para llevar la banda ancha al mundo rural porque usted dijo

pues la inversión por hogar en esta materia es muchísimo más elevada en el mundo rural

están encantados de poder acceder de la misma manera que un ciudadano de la calle dato a todas las ventajas y servicios que el acceso de banda ancha les permite

a veces más que informativo es inquietante es decir el mundo rural que aquí lo es menos rural que en otros lugares

dispone de recursos públicos siempre mejorables para la vida rural al menos en lo que a esos servicios públicos se refiere que no hablo de tener un zara al lado

es muy similar lo que se disfruta en el municipio rural

un problema es que se viene estableciendo exclusivamente un diálogo bidireccional entre mundo rural y administración

que lo tiene que ser pero el problema del mundo rural no es su relación con la administración que entiende y defiende ese mundo como ya les he dicho el problema es que los mundos rural y urbano muchas veces parecen separados

no saben ponerse en el lugar de quienes habitan en el mundo rural no puede ser que el urbanita que normalmente solo accede al mundo rural en momentos de ocio

de la vida en el mundo rural carente de la cercanía de algunos servicios

hoy en día al menos en la administración ese debate se ha superado y el ejemplo de desarrollo rural a pesar de que aunque es preciosa es preciosa como ley en su concepción

en su aplicación práctica por eso el gobierno se comprometió en el calendario legislativo en modificarla y por eso lo pedimos en nuestra transacción que lo haga pues esa ley tiene que ser el instrumento

asuma que el segundo requiere de una mejoría solidaria de sus servicios más que pedir a las administraciones que aborden el problema del mundo rural que en el fondo es un problema de equilibrio territorial pues las administraciones lo entienden

que agrupa a más del ochenta por ciento de la población vasca deje de expresarse

de los habitantes del medio rural y a veces demasiadas veces con superioridad y entienda que la existencia de los pueblos rurales

equilibrado socialmente un país que sabe mantener sus esencias originarias y un país que piensa que el futuro sostenible

ningún pueblo puede prosperar hasta que aprenda que hay tanta dignidad en labrar un campo como en escribir un poema

que apoyar el sostenimiento y el desarrollo del mundo rural es esencial para el mantenimiento y crecimiento global del país

les tengo que confesar que estoy alucinando estoy alucinando de una parte o sea de parte de todos los partidos

en esta campaña me ha acompañado y lo dijo el otro día y me la grave y es así

velocidad de banda ancha podemos tener unas televisiones

no podemos comprar una lechuga y por supuesto no nos podemos subir a ese autobús que pasa por delante de la puerta vacío porque no creemos en la rentabilidad social de las cosas

a este parlamento qué se puede debatir o no en esta cámara perdonen estamos trayendo un problema que el señor urkullu el propio lehendakari el otro día reconoció que existía hemos traído un problema que existe es más

algunos creo que ni siquiera se han leído la moción hayan acordado una cosa en las juntas generales de álava y cuando se trae aquí me digan que no tiene nada que ver o sea estoy pero dolida y avergonzada realmente desde luego euskal herria bildu acordó con el pnv hace dos años sacar

un informe sobre el tema del despoblamiento y el pnv estuvo de acuerdo se sacó se hizo y se hizo un diagnóstico y encima fue súper interesante entonces creo que en eso

pero hasta ahí poco más tengo que lamentar que relativicen el problema es que el problema existe es que esto se está vaciando es que los pueblos cada vez tienen menos personas es que el sector cada vez tiene menos personas

pero es que eso es así y no lo digo yo lo dijo el señor urkullu y lo oímos todos los días

su propio grupo juntero lo dijo el otro día todas las medidas

por favor al partido popular señora lópez de ocariz creo que no ha leído la moción de verdad y desde luego que esto no es españa yo lo tengo absolutamente claro

pero menos mal que no sirva de precedente compararnos con españa porque creo que la situación es mejor pero no por eso es buena

pero dónde están las oportunidades si no hay gente trabajando si no hay oportunidades o sea estamos pidiéndoles

es rentable porque no se puede vivir de él si nos quitan las ayudas es algo tan sencillo como eso porque nadie quiere trabajar veinticuatro horas al día mientras el resto trabajan de seis a dos

un poco de por favor hablando de transporte escolar transporte en la comisión de educación una y otra vez el partido popular ha venido a reclamar el transporte escolar y hoy usted aquí me dice que el transporte

para estar de acuerdo con la moción no entiendo por qué nos la van a votar en contra y bueno habla usted de rechazo de apocalipsis no yo no hablo de apocalipsis yo le estoy planteando una situación que es absolutamente cierta

y desde luego nada de eslogan y desde luego traer aquí el acuerdo presupuestario de diciembre para hablar del despoblamiento me parece que es

con el señor tellería bueno efectivamente el treinta y tres por ciento del pib de araba es industrial

de la comunidad autónoma vasca eso es así entonces miremos un poco con lupa la situación del resto de personas y del resto del territorio

de desarrollo rural solo se trata de políticas que tenga que meter el departamento de vivienda el departamento de transporte en definitiva que el gobierno vasco se implique porque es que es su obligación como gobierno que es es verdad nos dice ha metido cuarenta y tres millónes de euros

pues perdonen esto es más aún si quieren un fracaso el fracaso de un modelo de políticas de desarrollo rural que no ha servido de nada lo siento

y simplemente decir y remarcar que la moción que hoy creo que va a salir adelante desde luego nada tiene que ver con el tronco de la moción que era primera desde luego no habla de desarrollo rural y desde luego
nada tiene que ver con el tema que hemos intentado debatir hoy aquí eskerrik asko eskerrik asko

bueno yo creo que en este debate estamos oscilando entre si hay problema o no hay problema

los grupos que apoyan al gobierno asumen que hay un problema pero lo dicen como entre dientes para que no se note demasiado yo podría coincidir con el señor tellería que las razones por las que

por las que se vacían provincias enteras de españa pero que eso está sucediendo es así es un hecho real no hay más que mirar a las estadísticas de demografía y población y ante eso hay diagnósticos

una a una a las personas que viven en los municipios rurales y aquí no dice que esté todo mal como tampoco lo hemos dicho nuestro grupo ni el grupo proponente ni hemos planteado el apocalipsis lo que estamos diciendo es que las medidas planteadas hasta ahora no han funcionado y una de las cosas que más me gusta de debatir con el señor tellería es que al final acabo reafirmándome en mi discurso porque ha dicho el señor tellería que hemos dedicado un montón de dinero cuarenta y tres millónes de euros

que es exactamente la tesis que mantiene nuestro grupo si ese dinero se dedica como dice la señora lópez de ocariz a facilitar el emprendimiento yo estoy

es que en eso no tenemos ninguna duda pero sí quiero dejar constancia aquí que dinamizar económicamente el mundo rural no es dinamizarlo demográficamente no por asentar allí actividades económicas asentamos a población porque esa población además de querer trabajar y de que el trabajo sea rentable

ha dado en la clave necesitan compatibilizar una vida laboral y una vida familiar con servicios públicos de calidad

y tiene unos ratios más flexibles y el gobierno ha aplicado unos ratios más flexibles

tienen que ser unos ratios mejores y más flexibles porque el mundo rural

le aporta una serie de valores le aporta una serie de valores que son económicos también que son la conservación del medio ambiente que son la conservación del patrimonio

pero tendremos que reconocer que no están siendo suficientes si aún con todos esos ratios no estamos consiguiendo frenar esa despoblación

y un ejemplo es la digitalización si la digitalización solo nos va a servir para ver el sálvame en alta definición no hemos hecho nada

si no nos sirve para hacer educación a distancia si no nos sirve para teletrabajo para tele asistencia a las personas dependientes si no nos sirve para tener una aplicación en el móvil que nos permita a demanda activar un servicio de transporte público

si no nos sirve para eso la digitalización por mucho dinero que metamos no nos va a servir

me lleva a pensar en la transacción a la que han llegado los grupos que apoyan al gobierno con el partido popular porque básicamente lo que dicen ustedes es digitalización pero no dicen para qué y más dinero de la pac más dinero de la pac y yo en este acuerdo veo perfectamente al pnv y al pp pero no acabo de ver señor prieto al partido socialista más dinero de la pac para qué para qué está sirviendo el dinero de la pac ahora mismo en el mundo rural el dinero de la pac va a los grandes titulares

y esos titulares con ese dinero están comprando las tierras que se abandonan en los pueblos y están consiguiendo un acaparamiento de tierras y un acaparamiento en última instancia

de poder con el cual le van a dialogar el señor tellería y dice a dialogar no le van a imponer

son los grandes terratenientes los que están diciendo lo que se hace y lo que no se hace

en álava y veo al pnv también pero no les veo a ustedes y eso me sorprende

o se opongan a lo que han firmado o al menos se abstengan porque desde luego no es

de izquierdas apoye más dinero de la pac para favorecer a los terratenientes y a la concentración del poder en el mundo rural nada más gracias eskerrik asko becerra

efectivamente el transporte escolar está haciendo que muchas familias se deslocalicen

pero ese es uno de los temas fundamentales que ha hecho que muchas familias se

secundaria ya no puedes entonces la familia tiene unos hijos en unas condiciones otros en otros y efectivamente se deslocalizan

como el tema de la vivienda y la ordenación del territorio

y no hay vivienda de alquiler efectivamente en la vivienda también tenemos un problema pero mire no hemos hablado

sociales cómo se cultivan y especialmente en las juntas administrativas y usted sabe cuando un nuevo vecino agricultor o ganadero

de entrada tiene rechazo tiene rechazo sí por qué porque ya va ocupar va a ser uno más al reparto a los bienes comunales sí eso pasa eso pasa y le puedo dar nombres de pueblos entonces de entrada

que no vengan más que bastantes estamos vale eso pasa y hablan en su iniciativa que lo que dice la iniciativa es que el gobierno vasco cumpla la moción que se aprobó en juntas oiga

la mesa interinstitucional que ustedes han instado a la diputación no si le llaman a participar participará claro como el resto pero es que

entonces nos habla de eso si vas a una junta administrativa a decir que me voy a instalar esta producción probablemente en fin

también también eso también lo sabe usted y hay un punto que dicen de aspectos que tienen que

mayores consecuencia de las altas tasas de envejecimiento en las zonas rurales

yo le voy a decir lo que pasa en mi junta administrativa en la que yo estoy que voy al concejo hoy

han pasado un recibo a vecinos de noventa años por no acudir a veredas qué le parece

le parece bien y sabe por qué a unos sí y a otros no a los que sí les pasan es porque van los hijos a verles manda narices manda narices porque esos hijos hacen

públicos eso está pasando eso es real de hoy mismo

no quiere pagar esa sanción resulta que tiene que renunciar a que vayan a verle los hijos oiga

vaya y se informe eso pasa y usted sabe qué relaciones sociales se cultivan en algunas juntas administrativas sabe invitan

invitan a marcharse a desempadronarse por lo tanto vamos a ser realistas vamos a ajustarnos a la realidad y vamos también a ver qué actitud proactiva tenemos los agricultores los ganaderos y la gente que vivimos en los pueblos

presidenta señorías señor becerra no es necesario que proponga que la

para darme a mí alguna oportunidad porque ya le advierto desde ahora que vamos a votar los tres puntos

la votación por puntos que sea porque a usted le conviene alguno de ellos y tiene intención de votarlos sino

y mientras tanto mientras se lo piensa si pide la votación por puntos o no

que hay en el mundo rural en el país vasco para saber si es una política no progresista la de pedir que haya desde fondos europeos

el despoblamiento que es lo que plantea esto porque no estamos hablando de la pac

en un planteamiento que se escape a lo que es la política vasca sino que lo estamos haciendo dentro del país vasco y por tanto quizá lo que como decía

estuve tan ocupado en escribir la crítica que

y entonces quizás no ha leído bien lo que decía la enmienda y entonces le ha venido a usted pues no sé quizás la duquesa de alba o

y lo ha trasladado aquí bueno no es esa la situación usted lo sabe y por lo tanto en fin

tampoco viene mal señora lopez de arroyabe dice que está alucinada que está dolida que está avergonzada es que usted se alucina se duele y se avergüenza sola es decir

personal no lo transfiera a la cámara usted se irrita con una facilidad tremenda y además es que piensa que está autorizada en exclusiva a hablar del mundo rural y claro esto en fin una cámara en la que hay que hablar de todo

excesivamente pretencioso y eso le lleva a tener que exagerarlo todo y como todo lo exagera

uno no sabe en qué términos propone ese pacto porque claro si desde los grupos del gobierno como no puede ser de otra forma

y de dimensionar las políticas que se hacen usted dice que es que relativizamos el problema del despoblamiento es

usted alucinando avergonzando y doliéndose es que se aleja de los acuerdos y este es el gran problema que usted tiene pero no lo traslade a los demás cómo un gobierno no va a plantear en esta cámara

o que está haciendo en las telecomunicaciones o que tiene centros de salud y centros de enseñanza pública que atiende y que además muestra en el número de usuarios y en el número de alumnos que se está manteniendo en los últimos años

realidades y usted lo plantea como si estuvieran todos haciendo una marcha todos con el hatillo hacia la ciudad

hay que dimensionar los problemas porque además en el país vasco y en sector rural

es que hay zonas es que hay comarcas que tienen un potencial económico

de empleo y un nivel de vida muy bueno y que además así se reconoce

en el país vasco hay que intentar dimensionar las cosas pero usted no las dimensiona usted aquí está todo el mundo a lo suyo y claro nos quiere meter en un bucle que nosotros no estamos y no vamos a estar porque no obedece a la realidad y

es la realidad usted viene aquí a hacer poesía porque cuando uno quiere intervenir en la política cuando uno quiere influir en la política cuando uno quiere ser tenido en cuenta en la política condiciona las herramientas fundamentales

y lo hace en los presupuestos claro porque lo que hace una institución como este parlamento y lo que hace un gobierno es

de todos los gobiernos en todos los lugares pero claro ustedes estuvieron que sí que no que sí que no y la última hoja de la margarita era que no pero ese fue el problema

no ha habido acuerdo y en estos momentos las políticas que se traigan aquí en pnl en mociones en lo que ustedes quieran

que es la de con qué presupuesto se hace con el que han rechazado y esta es la poesía la poesía es venir aquí dar

aparentar que se dan lecciones pero luego no tomar decisiones de las importantes

y los números en decisiones pero todavía parece que está lejos de eso eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

eguerdi on no no me traslade la culpa de tenerla alucinada dolida usted a mí me tiene un poco desorientado

no sé lo que pretende de verdad no lo sé y mire señor becerra usted también a veces me desorienta

por lo menos pero hombre no se ha hecho solo las cosas con dinero yo recuerdo cuando se hicieron las primeras dot

y si el primer borrador era de un desarrollo digamos

cuanto más lejos estabas de la capitalidad menos tenías de servicios y de peso conseguimos desde el departamento de agricultura

con desarrollo reticular que se parece más al reticular que al centrífugo es decir

también el dibujo sobre el plano las ideas pueden ser ahora que lo más importante es el dinero también es verdad porque normalmente lo que se demanda es dinero o quizás les podríamos aprobar en los presupuestos cariño para los pueblos les podemos dar cariño a los pueblos eso es muy difícil lograr

porque en el fondo también quieren internet

pudieran ver netflix estarían protestando a que sí también para qué quieren internet además de para ver netflix y no pueden comprar el pan

para poder tener capacidad de generar empresas

allá ellos pero evidentemente para eso lo quieren y los pueblos miren no están tan mal miren el eustat

el último eustat del pib per capita de creo que es del año dos mil dieciséis

las comarcas más rurales de euskadi llanada alavesa ciento cinco por ciento valles alaveses ciento setenta por ciento

ciento cinco por ciento y rioja alavesa ciento noventa por ciento bien sé que es un dato un poco tramposo bien pero esa es la realidad el pib

eso es lo que hay y luego a partir de ahí cómo que no ha servido el dinero señor becerra para frenar la despoblación usted sabe por qué a pesar de todo como hay despoblación el dinero no lo ha frenado no usted sabe

estaríamos en una situación mucho peor porque el problema no es el despoblamiento rural es la obsesión que tenemos

ineficientes y un porcentaje elevadísimo de los que estamos aquí

importantes e ineficientes incluso escocia que usted lo ha puesto como un ejemplo

sabe dónde está la agencia que desde hace cincuenta años está trabajando como loca cincuenta años y ha conseguido algo sabe dónde está en inverness por si acaso los listos del programa viven en una ciudad de sesenta mil habitantes por si acaso

y por último lo debemos hacer fatal

lo hacemos fatal pero este debate que ha salido en un momento electoral por una campaña electoral porque se ha resucitado un tema de hace un año

solo les voy a recordar una cosa saben en álava el territorio más rural en las comarcas rurales quién ha ganado las elecciones

sabe cuántos ha sacado podemos cero eso para nosotros es una ratificación de que la política de desarrollo rural que hacemos está gustando que podemos mejorarla por supuesto como todo pero eso es el resultado después de un montón de años nos siguen votando a nosotros que ganamos en el territorio rural de álava una

la oportunidad en diversas ocasiones de debatir en torno al modelo turístico de euskadi desde elkarrekin podemos hemos querido siempre apostar por la reflexión y hemos incidido en la importancia de repensar las bases del modelo actual para ello es fundamental

y en el desequilibrio existente en las ciudades vascas de forma evidente en los cascos históricos

así como en algunas localidades costeras o de la rioja alavesa se está comenzando a vivir las consecuencias previstas e imprevistas

yo hablo cuando los demás se callen estupendo

vascas están comenzando a vivir las consecuencias previstas e imprevistas

por vender euskadi como un territorio de oportunidad en el mercado global de los operadores turísticos

se ofrecen como un producto que busca atraer inversiones que se traducen en el aumento de los flujos turísticos hacía el territorio afectado no se puede ignorar el impacto económico

de la misma manera que ocurre con el impacto ambiental social cultural y antropológico del mismo son efectos conocidos y estudiados durante las últimas décadas

y conocen los impactos negativos del turismo descontrolado tras el cambio hace unos meses en la dirección del departamento al frente del cual hoy se encuentra la señora pérez ezquerra nos parece un momento adecuado para afrontar la responsabilidad

que ayuden a combatir las consecuencias negativas de una gestión deficiente y de un fenómeno que como el turismo es sin duda global desde elkarrekin podemos ya hemos señalado en anteriores intervenciones que el debate del modelo turístico es también el debate sobre el modelo de ciudad y sobre la planificación urbanística

en la última década ha estado orientado como decíamos a la propia oferta turística

una apuesta evidente por el hormigón donde se siguen construyendo y proyectando viviendas y grandes infraestructuras el turismo supone el seis por ciento de la riqueza en euskadi

cuando fomenta flujos turísticos de manera descontrolada tienen un impacto negativo en la sociedad vasca y en el entorno natural no dejemos de lado el hecho de que el turista es un efecto más y en gran medida una víctima de las estrategias comerciales de la industria turística internacional

de los lugares visitados en detrimento de otras fórmulas menos rentables no se trata en ningún caso de demonizar la figura del turista sino de ampliar

economicista hacia un punto de vista más social no es difícil conocer algunas de las consecuencias sociales de las que hablamos no hay más que escuchar

las consecuencias y no podemos de ninguna manera

fijémonos por ejemplo en la precarización laboral de las trabajadoras del sector

de los centros históricos además de la búsqueda indiscriminada del aumento de turistas es causa directa de fenómenos como la gentrificación que se está produciendo

de las capitales vascas y que afectan directamente a la vida cotidiana de las vecinas y los vecinos en forma por ejemplo de su vida desproporcionada de los alquileres de las viviendas

de los pisos turísticos además de los problemas de convivencia que en ocasiones genera esta nueva forma de convivencia forzosa de modos de vida

que compran edificios enteros y los alquilan en exclusiva a turistas a precios desorbitados lo hemos dicho muchas veces hay que regular y controlar la actividad con medidas efectivas se aplican en otras ciudades mientras el gobierno ha tratado siempre cuando hemos sacado este tema de reducirlo todo a la dicotomía entre turismofobia

en las que las simplificaciones y la falta de rigor analítico van de la mano de campañas de comunicación

y de los impactos negativos del turismo en nuestras ciudades y pueblos que además se soslayan por socorridos mensajes de tipo

entre la gente en general no existe esa percepción de que haya saturación

no es ni barcelona ni mallorca pero existen unos impactos negativos que tenemos que reconocer y unas medidas que tenemos que afrontar

saben además que decir estas cosas no alivian en absoluto la situación en los lugares como en la parte vieja de donostia

ya que en estos sectores por ejemplo ven que su derecho a acceder a una vivienda se recorta aún más porque los alquileres se disparan y además

se encarecen la calidad de vida de las vecinas como ya hemos dicho antes esto lleva muchas veces que a las trabajadoras del sector del turismo

empeoran y el propio sector se precariza lo hemos dicho aquí muchas veces un turismo de calidad tiene que tener empleos de calidad

de la parte vieja de donosti allí residen de manera fija unas

y la oferta entre pisos turísticos apartamentos y hoteles es casi

camas lo que viene a ser un establecimiento hostelero cada

por este motivo se perderá todo su atractivo en efecto la sobreexplotación turística contrasta con otra realidad la falta de equipamientos para quienes viven allí durante todo el año

en el turismo lo que genera aún más enfado y preocupación por parte de las vecinas otros datos que están contrastados y que muestran el alcance de este fenómeno y que nos deberían hacer replantearnos y repensar el modelo turístico que queremos tener en euskadi es por supuesto el fraude de los pisos turísticos como hemos sabido

misma cámara y como hemos tratado muchas veces además las cifras de la economía sumergida en el sector turístico que como sabemos es una de las más altas en relación con otros sectores económicos y resulta llamativo que prácticamente una de cada cinco inspecciones realizadas en empresas vascas en los últimos cuatro años han encontrado personas que o bien trabajan

o lo hacen más horas de lo fijado en el contrato hablamos de contratos fraudulentos que se repiten habitualmente y especialmente en verano

el resto de la jornada horas extras no pagadas jornadas completas sin declarar etcétera

en que las personas viajeras deberían contribuir a un encuentro social y cultural con las clases populares de la ciudad y además no es una opinión aislada

y estudios que concluyen que hacer un turismo y unos viajes más ralentizados y pausados menos masificados y más sostenible es hoy por hoy una respuesta posible al problema de la difícil compatibilidad entre el crecimiento cuantitativo

y los impactos sociales económicos culturales y medioambientales negativos estos flujos turísticos queremos que se promueva un modelo de gestión turística que contribuya eficazmente al mantenimiento y protección del patrimonio cultural y natural

el desarrollo sostenible y se promueva la autenticidad sociocultural

con organizaciones no gubernamentales y con productoras y artesanas locales en los diferentes destinos un turismo en definitiva inclusivo integrador y que no excluya a nadie

los bolsillos y a todas las economías el fenómeno del turismo

la atención de los medios de comunicación a propósito de acontecimientos de toda

en profundidad es decir un debate fundado en el análisis y el contraste de ideas y no en declaraciones altisonantes titulares simplistas y meras declaraciones

que responde a un modelo turístico de grandes eventos e inversiones que no repercute en la economía local

ha sido escaso más allá del crecimiento desmedido en los precios en hoteles apartamentos pisos turísticos bares restaurantes y demás espacios de ocio así como el caos en el tráfico y la privatización de parkings públicos y no mencionamos

euroliga la organizadora del evento y de las administraciones públicas de sostener

de trabajo precarias este es un ejemplo del modelo turístico que estamos fomentando porque vuelvo a repetir en ningún caso y hay que señalarlo el problema son

la verdad no se diferencian en absoluto de las personas que viven en los municipios vascos las consecuencias que se derivan del aumento en el número de visitantes algunos de los cuales

un motivo lógico de preocupación la condición turista si se nos permite es causa y efecto de cambios en el paisaje de ciudades y de pueblos

ciudadana que no le gusta tratando de reducirlo todo desde las instituciones

en euskadi el sector turístico aún tiene margen y no hay esa percepción

una situación como en otras ciudades o en otros municipios a nivel internacional pero sí hay unos indicadores de unos impactos negativos

ante los cuales tenemos que poner medidas para no llegar a esos límites

ciudades en definitiva si no tomamos las medidas oportunas el crecimiento del número de turistas indiscriminado traerá consecuencias negativas al sector turístico y entendemos desde elkarrekin podemos que más vale prevenir más vale ponernos manos a la obra que seguir lamentándonos

reflexionara sobre el impacto medioambiental económico social y cultural de los fenómenos turísticos en algunos puntos de euskadi

los estudios y análisis existentes sobre las consecuencias negativas y las reivindicaciones de la sociedad civil entendemos además que los centros urbanos y cascos históricos de ciudades de nuestra comunidad así como algunas localidades costeras de euskadi

se está imponiendo y además los flujos turísticos y el crecimiento desmedido y ante la inacción y la falta de coordinación interinstitucional no

y facilitando un modelo turístico que se basa en el primer sector donde se priorizan las exigencias del mercado de las grandes multinacionales y de los operadores turísticos en detrimento de la calidad de vida de las personas que habitan

de nuestra comunidad porque además entendemos que no es incompatible el crecimiento con la sostenibilidad y por ello hoy traemos una moción y una propuesta una enmienda de transacción en la que pedimos cuatro cuestiones fundamentalmente una que se impulse no que se siga trabajando que se impulse un modelo turístico sostenible social

medioambientalmente sostenible con el entorno que sea equilibrado que sea diversificado y respetuoso

como por supuesto de las turistas y de las trabajadoras del sector además entendemos que tiene que ser un proceso participativo

los agentes del propio sector y que además cuente con la colaboración de todas las instituciones

administrativos porque además entendemos que en euskadi hay una oferta única diferente peculiar particular

identidad y que hay un conjunto de atractivos y particularidades

que tenemos que exponer y que tenemos que poner en valor en tercer lugar

de las naciones unidas con el fin sobre todo de desarrollar un desarrollo o de llegar

y poner en marcha políticas que tengan en cuenta estos impactos negativos ante un crecimiento desproporcionado y desmedido de la actividad turística y por último y ante

entendíamos que había que elaborar un informe sobre la situación de los pisos de uso turístico realizando una radiografía cuantitativa y cualitativa de este sector así como la evolución del mismo sobre todo en los últimos años y que fuera

y entendemos que con esta propuesta estábamos en la línea de lo que muchas veces hemos hablado aquí

teníamos o estábamos de acuerdo en que es evidente que con este nuevo modelo turístico las consecuencias negativas si no tomamos medidas ponemos o impulsamos políticas que realmente nos lleven a tener un turismo sostenible los impactos negativos cada vez los iremos notando más y entonces perderemos todas

gracias señora presidenta señora consejera señor consejero señora garcía

y que como usted misma ha dicho una moción que hace referencia al modelo de turismo que

y en estos dos años sí que hemos avanzado yo creo hemos profundizado en algunos aspectos y ya habíamos llegado a algunas conclusiones en cualquier caso

usted en la moción dice que el gobierno cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible que elabore modelo que impulse un modelo turístico respetuoso y sostenible social económica y medioambientalmente y que se haga de manera participativa con la ciudadanía y los

visto así individualizado pues todos estamos de acuerdo porque esto es pues y la paz en el mundo pues bien sí pero como le digo yo creo que habíamos

puesto ya otros aspectos sobre la mesa y sobre iniciativas que hemos aprobado en esta cámara y el problema es la justificación de la iniciativa y he visto que

y nos traslada unos datos que por lo que yo he podido ver

no compartimos nos habla de un crecimiento desproporcionado y desmedido de la actividad turística

que hablemos de turismo de turistas y hablemos de excursionistas y si nos vamos a los datos que tenemos del pib en el conjunto del país vasco del turismo es del seis coma uno cuando en el resto de españa la media es del catorce coma seis si vamos a álava es del cinco coma uno por ciento en bizkaia del cinco coma cuatro por ciento en gipuzkoa el siete coma seis por ciento

ciudad es del quince por ciento de excursionistas no tenemos datos hay algunos datos pero que no dan una referencia de un porcentaje

yo creo que con estos datos podemos ver que nos movemos en datos muy

es donostia quien presenta el núcleo urbano de mayor afluencia turística que coincide con un atractivo idóneo también para el excursionista los datos de donostia nos dicen que en dos mil diecisiete el crecimiento de la actividad turística disminuyó respecto a los datos de dos mil dieciséis

estos datos también hay sus picos la realidad es que el peso del turismo fuera de donostia es bajo en el territorio de gipuzkoa como pasa en álava y en bizkaia

genera cohesión social lo que es básico es

lo que usted decía el modelo sostenible cómo hacer un seguimiento continuo

el por qué se producen determinadas concentraciones en determinados puntos y a determinadas horas eso es lo que pasa

eso lo dicen yo me he leído la ponencia que hubo en las juntas generales todas las exposiciones las conclusiones

las comarcas del territorio creo que ha sido una ponencia un trabajo profundo pero una ponencia por lo menos para mí muy enriquecedora muy didáctica

y al final lo que queremos buscar es cómo dinamizamos

cómo planificamos esa gestión del turismo del turista

cómo diversificamos la oferta y cómo creamos nuevos productos turísticos basados en los recursos que los tenemos

y luego la coordinación entre los agentes públicos y los privados para impulsar

de manera que no se produzcan esas concentraciones que se dan como le decía en determinados puntos a determinadas horas

que primero es la ordenación turística después es la dinamización

y a veces las instituciones se lanzan a la promoción sin haber una programación básica una ordenación turística y por eso son necesarias medidas para la deslocalización del turismo

con el fin de generar flujos como le decía mucho más ordenados y fáciles de gestionar

a tener en cuenta ha descendido el incremento del turismo del sol y playa

con un crecimiento del siete por ciento pero ha aumentado un veinte por ciento el turismo y eso es muy importante también no esa tendencia merece un control merece una atención merece que

y que diversifiquemos la oferta para mover los flujos

produzcan esas concentraciones en determinados puntos es decir evitar la masificación que se produce en algunos momentos donostia tiene una singularidad también la parte vieja que hacia usted referencia tiene un establecimiento

por cada veinticinco habitantes cosa que es singular tiene mucha concentración eso también

cómo reordenamos las actividades eso invita a que efectivamente en determinados momentos allá una confluencia de

a comer a cenar y confluyen en la misma zona porque hay mucha oferta concentrada por lo tanto tiene cierta lógica era muy interesante lo que decían desde el observatorio del turismo vasco que está gestionado por el departamento de turismo de la universidad de deusto

inteligentes para facilitar la gestión del sector turístico es decir herramientas para una buena gestión del turismo esto también lo habíamos hablado aquí en algún momento cuando hablamos del observatorio del turismo y por qué era imprescindible y necesario que estuviesen activos y que tuviesen

es parte importante del éxito de que el turismo confluya de manera

no moleste o no afecte o afecte lo menos posible a la ciudadanía del entorno

el observatorio que tiene pocos datos a nivel local y comarcal por lo que

también decían que carecían de información sobre los excursionistas lo que hace difícil llevar un control y es verdad san sebastián siempre ha sido

pues genera picos de alta concentración claro que sí

también solicitaban la colaboración interinstitucional para el intercambio de datos como decía la representante de este observatorio decía

una buena experiencia del turista y que en definitiva seamos un destino

desde el grupo popular hemos querido plasmar en nuestra enmienda la necesidad de la coordinación interinstitucional de los agentes implicados y de la sociedad civil porque yo creo que también la sociedad civil que vive y habita en determinados ámbitos donde se pueden producir los picos

saber qué se está haciendo y por qué pasan algunas cosas que no deben de pasar que participe que opine y que tenga conocimiento

todo esto como les decíamos y como decíamos en la enmienda para que vaya hacia un modelo de turismo sostenible y ordenado

siguiendo con la colaboración interinstitucional conseguir integrar todos los atractivos turísticos y eventos culturales es cómo promocionamos nuestros productos y que tenemos que promocionar no solo aquellos estrella

que vaya conjunta que todas las administraciones vayamos de manera unida para

porque eso nos ayudará a controlar los flujos y a controlar que no se produzcan esas altas concentraciones en determinados puntos y en determinados momentos nuestra

de colaboración y de profundizar en lo que usted llevaba un modelo turístico como lo decía pues sí compartimos sostenible

con una colaboración interinstitucional social y de los agentes implicados que nos lleven a hacer a ordenación o una programación

muy importante y sobre todo en donostia el excursionismo porque sí que genera picos de afluencia alta en determinados momentos que ayudan

puntos de alta concentración que queremos evitar todos los queremos evitar por lo tanto hemos llegado a una enmienda con los grupos

creo que es una enmienda que también hemos aportado algo que ustedes nos decían de

de este sector así como la evaluación del mismo y que lo remita al parlamento me parece que

parte de estos datos ya los tiene el gobierno pero nos parece importante contar con esta información

como le decía nuestra iniciativa no es que tengamos dos modelos el modelo es el mismo

activar todos los mecanismos de control y de orden para que la experiencia del turista sea positiva y podamos ser competitivos
en el sector turístico que es el objetivo que debemos de conseguir nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea

poco conocida los titulares hoy son el magnetismo de rocadragón

visitaron el enclave de una maravilla poco conocida

por un estallido incontrolado de los flujos turísticos

las franquicias se llevan por delante la especulación la subida de los precios de los alquileres

y van dejando un vacío que van ocupando las franquicias esto nos está pasando con el comercio tradicional y está pasando también con la hostelería y esto empieza a ser grave porque nos tocan los bares y esto en euskal herria

la hostelería tradicional que bromas aparte es un espacio cultural un espacio social está desapareciendo en el casco viejo de bilbo por un fenómeno de eclosión

a un escritor anónimo que no es un portavoz de eh bildu ni de elkarrekin podemos y

esto lleva camino en convertirse en un parque temático para turistas ojalá me equivoque

y si perdemos la esencia esto acabará pareciendo la parte vieja de san sebastián que me perdonen los donostiarras pero hace unos años cuando se ponía ejemplo de ciudad

luego ámsterdam y ahora un bilbotarra normal y corriente pone como ejemplo de espacio donde se ha perdido la esencia y la identidad la propia parte vieja de donosti y es que veamos los datos en donosti algunos han apuntado anteriormente en la parte vieja viven seis mil personas

un establecimiento hostelero cada dos portales doscientos diez en total

hosteleros en el barrio que en el resto de la ciudad y luego pasa lo que pasa porque

los atascos de población pero el efecto y el impacto alcanza a toda la ciudad

un veinte por ciento en el año dos mil dieciocho y en los cuatro últimos años se ha encarecido un treinta y tres por ciento y no solo exclusivamente en relación con la turistificación

a esta proliferación indiscriminada de oferta turística no se ha puesto coto y se podía haber hecho con los pisos turísticos y también con los hoteles mediante moratorias y normativas específicas destinadas a reducir ese impacto y eso se puede hacer

siguiente escala ámsterdam en ámsterdam se prohíbe la apertura de tiendas para turistas

se prohíbe en ámsterdam en la zona centro abrir más tiendas para turistas

no lo que pasa es que como decía aquel no solo de helados vive el hombre

también necesita comprarse comida y si todas las tiendas son para los turistas y para los helados pues evidentemente no se puede vivir se pierde enormemente calidad de vida pero mirad también lo que han hecho en ámsterdam ya no solo calidad de vida sino también es identidad cultural

repito si esto lo propone euskal herria bildu nos sacan a relucir a zumalacarregui lo paletos que somos lo pueblerinos unamuno y ese complejo de superioridad que tiene el nacionalismo español pensando que los demás somos de pueblo y ellos son los cosmopolitas

es una ciudad holandesa que es el país de europa no anglófono donde más inglés se habla porque estos no están cerrados al mundo porque estos quieren tener la oportunidad del inglés para sus hijos para el estudio para el enriquecimiento cultural pero lo que no quiere es perder su identidad propia y han prohibido las tiendas de helados en el centro y han prohibido

rotular en inglés lo dicho lo que teníamos que haber oído si lo hubiéramos propuesto nosotros

movilizaron ciento veinticinco autobuses yo creo que las crónicas del desembarco de normandia tenían menos literatura épica que esto porque una marea de cerca seis mil cruceristas inundó ayer parte de bilbao

ansiosos por conocer los atractivos turísticos ciento veinticinco autobuses para traslado en excursiones

a la parte vieja de donosti a comer pinchos y a san juan de gaztelugatxe y al guggenheim

que se está promocionando en este país por cierto me encuentro entre tanta papelería es difícil seguir el orden bares y restaurantes reciben con recelo la nueva ley de horarios la mayoría de los negocios

hostelería tradicional que está siendo cerrada y desplazada

da pie a estas franquicias que luego tienen que recurrir a la explotación y a la piratería laboral

y su gobierno que elige como el elemento central de la oferta turística vasca la gastronomía

se está equivocando porque la gastronomía existe aquí pero no es el hecho diferencial vasco la gastronomía la buena gastronomía existe aquí

existe en japón existe en muchos sitios saben lo que es exclusivo propio de este país en una época en la que buscamos un turismo diferenciado precisamente

en otro lugar del mundo pues euskal herria precisamente su cultura su idioma su historia sus tradiciones y eso es lo que debe ser

la gente viene a buscarlo y se lo tenemos que dar si ofertamos turismo de masas para comer pinchos al final damos pinchos de masas y los propios pinchos de donosti están perdiendo su esencia en las tabernas tradicionales y están siendo sustituidas por otras en cambio si ofertamos autenticidad cultural el que venga vendrá buscando autenticidad

estaremos obligados a conservar esa autenticidad conocerán la fuente de neutrones de espalación ess bilbao porque aquí hemos debatido muchas veces

trozos de algo impactando percutiendo con otra cosa y la fuente obtiene efectivamente neutrones espalando átomos espalar también

contra otra para sacar lascas de siles y hacer puntas de flecha

evidentemente no eran nuestros antepasado los que espalaban en la prehistoria

pero en este país se lleva haciendo cosas durante muchos años y hay una continuidad cultural y hay una serie de tradiciones y hay una serie de riquezas idiomáticas y de otro índole que es

ha surgido algo que se llaman euskal herria y queremos que el turismo además de hacer una aportación económica también sirva para conservar nuestra identidad

a acabar la exposición pero simplemente dos cuestiones el turismo tiene un valor económico importante el turismo tiene un valor cultural importante de intercambio no solo para el emisor no solo para el que viaja sino también para el que recibe al turista no vamos a poner nunca en cuestión

desde la perspectiva del ocio y del descanso el turismo es imprescindible y el turismo es necesario en una sociedad moderna y también recibir turistas pero hay que saber equilibrar

que contratiempos porque a veces también se puede caer en la tentación de hacer el dinero fácil a corto plazo y pensar que el turismo puede sustituir a otras actividades económicas mire se han hecho dos estudios

evolución de la economía en las diferentes autonomías del estado y los dos son muy coincidentes esta es la evolución sobre la base cien de cada una de las comunidades del estado

en los últimos veinte años canarias y baleares es decir las autonomías que se han centrado exclusivamente en el modelo de turismo son las que han perdido mayor renta con respecto a la media y este es el informe del ine y este es el informe de las cajas de ahorros

a la renta por tanto incluso desde una perspectiva economicista el turismo hay que manejarlo con mucho cuidado porque a corto plazo puede ser muy jugoso pero a largo plazo puede tener problemas terminamos el viaje en gaztelugatxe

y ella lógicamente no tiene ninguna culpa de hecho en las islas baleares está en peligro de extinción

yo no quiero que nuestro pueblo termine como la lagartija de gaztelugatxe desplazada y extinta y no quiero que el turismo

de cambiar las políticas tanto de evitar que esa masificación que ahora se da en focos puntuales se extienda e incluso también estamos a tiempo de revertirla en aquellos
si se trabaja bien se puede revertir eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

presidenta consejera por empezar por el final en

la tenemos además en la zona de igeldo concretamente con unas charcas maravillosas

determinadas especies eso en un lugar en el que el turismo parece ser que es masivo y que en fin

de cómo hacer bien las cosas al menos los donostiarras miren

podemos deriva de una interpelación que ese grupo presentó en el año dos mil diecisiete en octubre de dos mil diecisiete y señora garcía desde octubre de dos mil diecisiete al día de hoy ha llovido

y el gobierno vasco al que usted dice que le falta gestión y que no realiza programas ni actuaciones y que las que realiza parece que van en contra de ese modelo turístico sostenible por el que usted aboga pues desde aquel momento

el gobierno vasco tiene un plan estratégico de turismo comercio y consumo tiene un plan director de turismo los ayuntamientos en eudel se ha tratado la cuestión

ordenanzas municipales para regular lo que son las viviendas de uso turístico tenemos la ley de turismo en plena marcha además con pleno cumplimiento por parte del gobierno vasco es decir

en esto del turismo han hecho ustedes y usted concretamente señora garcía además de la iniciativa una exposición bastante catastrofista y a mí me daban ganas de responderle con la intervención que realizó el consejero entonces retortillo aquel octubre de dos mil diecisiete a su interpelación porque francamente nos ha leído usted aquella moción de cabo a rabo

ni siquiera en los datos y la verdad es que me parece

un diagnóstico muy concreto de cuál es la situación del turismo a día de hoy qué es lo que se ha trabajado cómo están trabajando las instituciones

para poner medidas y mire yo me voy a fijar en un hecho exclusivamente en gipuzkoa en la provincia de gipuzkoa esa que tiene la capital que

en la que el turismo está absolutamente masificado usted hablaba en su moción e incluso en la enmienda que ha transado de un turismo desproporcionado de un turismo

a iniciativa del grupo socialista se creó una ponencia para debatir todas las políticas que se estaban llevando a cabo en materia de turismo y sabe usted qué grupo

en contra a la totalidad de todas las conclusiones porque hubo grupos como euskal herria bildu que en aquel momento planteó un voto particular a algunas cuestiones que quedaban según ellos mal reflejadas o no bien

el grupo popular vasco también planteó un voto particular con el tema de la tasa turística explicándolo es que fue elkarrekin podemos

el único grupo de todas las juntas generales de gipuzkoa que decidió ponerle el veto a esa ponencia y a las conclusiones de esa ponencia sobre turismo

de magníficos titulares en algunos casos pero que luego lo que es el contenido del discurso se va usted a frases demoledoras que derriban absolutamente esos magníficos titulares de queremos un turismo sostenible

que no nos achaquen a nosotros que realmente no velamos porque el turismo tenga controles tenga inspecciones y luego señora garcía

alarmista me pone como ejemplo y me da datos que además no son

el señor retortillo y todavía hoy hay más estudios que avalan que dicen que donostia no está masificada que no tiene un turismo masificado

pues los datos hasta ahora los datos rigurosos de los observatorios no vienen a decir

ni que hay un turismo desproporcionado ni desmedido pero evidentemente no podemos quedarnos en la cuestión de bueno aquí no pasa nada y por lo tanto no hay nada que trabajar hay mucho por lo que trabajar y por eso desde el gobierno vasco se está llevando a cabo una tarea

en la que se intenta compatibilizar la promoción turística

ni caer exclusivamente en la promoción turística lo que hay que hacer como bien dice la enmienda que hemos transado con el grupo populares vascos lo que pretendemos es planificar

desde un orden interinstitucional hacia un modelo de turismo cada vez más sostenible porque nos parece que ese es el camino a seguir porque no podemos

por si acaso hay amenazas porque el turismo tiene amenazas tiene desafíos pero no tiene una realidad masificada hoy en euskadi nos pongan las fotos que nos pongan hoy no hay datos no hay índices que nos vengan a decir que el turismo está masificado

ni en álava ni en euskadi en general tenemos turistas y unas posibilidades de crecimiento

importantes pero nadie está abogando por ese crecimiento turístico desmedido y sin control nadie y si se generan problemas que son problemas que vienen de antaño el alquiler en donostia no está caro

ni está caro desde antes de ayer ni está caro desde hace unos pocos años

muchos años porque la política especulativa sobre el tema de la vivienda

a que realmente se encauzara el tema del alquiler como una cuestión excepcional porque todo el mundo quería tener un piso en propiedad pero eso son cuestiones urbanísticas el turismo no es el culpable

y habrá que poner medidas claro que sí con respecto a las viviendas turísticas por eso también lo señalamos en la enmienda por eso en aquel entonces hace un tiempo también se vino a

sobre cómo afectaba el tema de las viviendas turísticas es decir que puede haber inconvenientes puede haber cuestiones que sean de índole

pero que hay que atajar porque oiga se imagina usted que los del barrio de amara

nos pongamos fervorosamente en contra de la real sociedad de los

y decidamos que no haya más partidos de rugby porque oiga es que nos molestan

y nos molestan para hacer los partidos de rugby internacionales y a nivel de copa mundial y sabe qué le digo que también si la real llegase

encontrarse en ligas europeas caramba a los de amara oiga nos fastidiaría muy mucho que realmente viniese tanta gente

pues le digo a mí no a mí no me molesta y vivo en el barrio de amara y la verdad es que me parece que hay que tomar las cosas con cierta relatividad porque si no

pueden ser discursos alarmistas y

fuera de lugar con todos mis respetos pero fuera de lugar porque nos ponemos en una situación absolutamente radical y ni ponemos ni proponemos medidas que puedan atajar esos determinados acontecimientos puntuales que pueden ocasionar ciertas molestias

como no pero oiga que son molestias que por un bien común y por un bien general pues merecen la pena tener esos acontecimientos deportivos culturales

patrimonio histórico cuál cuál me gustaría conocerlo

del tema de la destrucción del patrimonio histórico de la parte vieja qué nos hemos cargado en la parte vieja qué nos habremos cargado yo

que el gobierno vasco lleva trabajando está trabajando y seguirá trabajando por ese modelo de turismo sostenible

que tenemos mecanismos para controlarlo que tenemos además voluntad política para hacerlo que no existen datos que hoy en día nos puedan llevar a pensar que donostia o algunos otros lugares de otros territorios históricos estén en el mismo

ni de turismo masificado ni siquiera de muchísimo turismo como pueda ser venecia ámsterdam que aquí se ha comentado

nada por el estilo porque no tenemos un turismo de sol y playa nunca lo hemos tenido y no creo que por mucho cambio climático lo vayamos a tener por lo tanto creo que hay que ceñirse

en euskadi y seguir trabajando en esas pautas del turismo sostenible

más que de una promoción turística pero una cosa no es incompatible con la otra estamos por la labor de que los agentes sociales y que los agentes del sector turístico colaboren en esa adaptación del turismo a los objetivos de desarrollo sostenible

en que las viviendas turísticas puedan tener un dosier que nos venga a decir cómo ha evolucionado este asunto desde que no había prácticamente ninguna regulación hasta hoy que se ha puesto en marcha ya desde hace unos años la ley de turismo se han puesto en marcha las ordenanzas municipales y por lo tanto nos estamos encontrando

viviendas turísticas en las que se han regularizado otro tipo de pisos también turísticos y por lo tanto conocer la situación

al menos el diagnóstico y la experiencia que nos han venido dando los datos hasta la realidad de hoy

un poquito de mesura en lo que son los diagnósticos porque solamente desde esa mesura y desde esa prudencia podremos adoptar las medidas entre todos más adecuadas y más acertadas
si no erraremos el tiro pero vamos de cabo a rabo nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera anderea euzko abertzaleak

hartu oso demagogikoa gaztelugatxe bai jakina y pone el grito en el cielo sí

lo mismo que se regula el flujo de personas a un determinado museo a un determinado parque a un determinado aquarium o a otro tipo de cuestiones o de realidad que resultan atractivas para el turista se regula

le ha dejado nublado bilbao sí ya sabemos

en los que se van renovando pero en ese caso y en el caso de bilbao y la noticia que usted ha enseñado aquí es un problema de relevo generacional cómo impide usted que

de un determinado restaurante cuyo propietario era su abuelo su bisabuelo decida en un momento dado

cómo lo impide no lo sé cómo lo va a impedir

el ayuntamiento de donosti que está gobernado por el partido nacionalista vasco y no solo preocupado

y las va a seguir tomando y en consonancia además con los habitantes de ahí y termino también tan obcecado con donosti que por mí también si la real llega a la champions y la gana encantado de la vida y yo también he vivido en amara y mi ama vive en amara y veo el campo desde casa pero

el problema o la cuestión del alquiler en donosti no viene provocada por el turismo ese es otro problema bueno por lo tanto no sé un poco

sabemos que el turismo tiene sus aspectos negativos el gobierno vasco y las instituciones vascas están trabajando sobre ello también el sector

evidentemente a las cuestiones que puedan surgir que surgen como en cualquier otra realidad de la vida eskerrik asko

eskerrik asko bueno pues vamos a empezar señora lópez de ocariz

de verdad no tiene ningún inconveniente con la enmienda de transacción

que los argumentos que usted tiene para no transar con nosotras no tiene absolutamente nada que ver

lamento mucho que hace veinte días seguramente usted lo hubiera firmado y hoy no y esa cuestión es

yo entiendo que cuando uno no tiene nada que decir o no sabe cómo argumentar lo único que hace es lanzar al oponente en vez de ideas y argumentos y razones y datos

de alguna forma que si el discurso del otro es catastrofista alarmista lamentable demoledor bueno creo que usted ha sido la más alarmista

que entiendo que son para esconder la falta de argumentos porque usted ha hablado de planes en estos dos años y es verdad

pero es que durante estos dos años ha habido una subida de alquileres ha habido una desaparición de los comercios tradicionales ha habido una aparición de franquicias excesiva

del espacio público de forma masiva en algunos puntos y municipios de euskadi y qué ha hecho ante esto el gobierno vasco presentar planes y le invito de verdad a que usted

y mire los precios y le invito también a que lea los informes que hablan de que las vecinas de donosti se tiene que ir del casco viejo porque no pueden hacer frente a los alquileres y luego si quiere viene usted aquí y me da argumentos a que hecho un ojo a los salarios que cobran las trabajadoras de las franquicias las trabajadoras

las camareras y lo que viene a ser además lo que está formulando un modelo de empleabilidad que yo entiendo que no es digno si para usted es digno

pero entiendo que no lo es ustedes no están haciendo nada para prevenir lo que se viene nada

para seguir atrayendo turistas a los cascos históricos que sí están masificados apostando por la cantidad

yo estoy hablando todo el rato de un modelo sostenible y una cosa es que la intención queramos un modelo sostenible pero que luego en la práctica

de verdad se haga efectivo porque claro luego también está el impacto ecológico usted sabe cuántos vehículos y emisiones de ce o dos general el impacto del modelo turístico y

porque nosotras tenemos muy claro qué modelo defendemos y es el modelo que hemos en nuestra moción muy concreto además ustedes hacen planes hablan están haciendo trabajan siguen en ello pero es que en enero en enero de dos mil diecinueve en este mismo parlamento ustedes se comprometieron a traer un informe de la relación entre el incremento de los pisos turísticos y la subida del precio de los y dónde está ese informe dónde está ese informe porque igual sí que me pongo catastrofista dónde está dónde está porque yo le estoy hablando de informes de datos

lo que me da a entender es que ustedes quieren que las ciudades estén al servicios de los touroperadores eso es lo que me da a entender y no

lo que ustedes quieren es convertir a euskadi y a sus capitales en destinos de inversión al precio que sea y al precio de qué al precio de precarizar los empleos

de sus propios barrios y al precio de destruir el patrimonio cultural y antropológico y qué patrimonio se ha destruido pues yo lamento que usted no haya sido participe

de la ley que aprobamos hace unas semanas porque además ha sido una ponencia muy interesante en la que no sé si los sabe pero a propuesta de elkarrekin podemos se ha de alguna forma

que son patrimonio cultural eso también es patrimonio cultural y contra ese

yo entiendo que también dicho esto nosotras en la moción porque yo tengo las dos enmiendas en la mano y a mí me cuesta

y si así lo hacen estupendo porque son dos propuestas muy muy similares la diferencia es que ustedes en vez de hacer un ejercicio

cuando les estoy preguntando por informes les estoy preguntando por

si de verdad queremos un modelo sostenible y estamos de acuerdo en eso y además no dudo de que estemos todos de acuerdo

que no haya luego otros intereses que nos puedan si es así y viendo de verdad las dos propuestas yo creo que alguno o alguna parlamentaria se va a equivocar al votar porque son prácticamente iguales

a decirle a usted que si usted rechaza una o dice que sí a la otra yo voy a pensar que usted no quiere transar conmigo

y bueno bienvenido sea pero lamento mucho que en este caso

de votar por puntos y a tiempo están de equivocarse y votar lo mismo que van a votar
que es la propuesta que hoy traemos eskerrik asko garcía anderea

garcía yo también me pregunto por qué no hemos llegado a un acuerdo por unanimidad cuando dos textos redactados

coinciden de tal manera que no se puede llegar a uno si me dice que son similares y nos vamos a equivocar no

vamos a ver yo creo que lo he dicho antes apostamos todos por lo mismo usted dice que apostamos por un modelo sostenible o

y le he dicho los tres parámetros que debe de regirse que hay que tener

y cuando vienen determinadas concentraciones en puntos reiteradamente es porque no hay ordenación y no hay planificación y para eso tienen que estar las instituciones tienen que estar los agentes y también la sociedad del entorno por lo tanto

hay que mejorarlo porque hay puntos que son críticos y que generan determinados problemas se quejaban de las franquicias mire yo

solo le llegan ofertas de franquicias las rechaza porque él quiere ofertarlo a alguien de aquí sí pero cuatro años sin cobrar un alquiler vale de per se vamos a ir nosotros a salvarle el local qué vamos a hacer

de verdad hoy hay determinados trabajos y determinadas actividades

que no las hacemos los vascos no

la hostelería es complicada requiere mucho tiempo y queremos

y entonces eso o lo hacen franquicias o lo hace gente inmigrante

y ahí es donde estamos pero porque nosotros elegimos es una elección que estamos haciendo nosotros rechazamos determinadas actividades

y en eso estamos como les decía creo que tenemos que comprometernos

a gestionar y ordenar la ciudad turística porque si no podemos llegar como decía un experto a que españa se convierta en un gran bar de pinchos y copas

y eso genera poca actividad económica genera actividad económica

por lo tanto como les decía ordenación dinamización y promoción y en eso tenemos que estar pico y pala y efectivamente

de agentes de instituciones casi permanentemente abiertos para saber qué pasa y hacer balances pero creo que el turismo que nosotros tenemos y la oferta que tenemos no tiene nada que ver con lo que se da en determinados puntos

no es real por lo tanto hagamos una gestión

para que no tengamos puntos que no sean sostenibles o picos de actividad

no es solo un problema de transmisión el de los locales vuelvo a leer

repito de eh bildu ni de un periódico especialmente crítico la

en su caso los diez empleados que trabajan en este negocio sufrirán las consecuencias de la fiebre inmobiliaria que vive el casco antiguo invadido a casi todas las horas del día por hordas de turistas

se no está yendo todo dejando entrar a las franquicias a tope y perdiendo lo nuestro van a llenar el casco viejo de locales impersonales donde solo eres uno más esto es vox populi esto es lo que está hablando la gente no hay más que darse un paseo por el casco viejo igual en donostia

de bilbo está cambiando a ojos vista de una semana para otra y está pasando delante de nuestras narices y eso es una pérdida de patrimonio cultural y a eso se puede hacer cosas mira gaztelugatxe decía el señor pues se regula quién regula quién ha puesto en las carreteras carteles señalando dónde está gaztelugatxe

hacia un sitio que ya está masificado quién pone esas señales quién ha coordinado el plan de gaztelugatxe qué ha pintado el gobierno vasco en esto

nada aquí cada uno hace de su capa un sayo y los resultados son los que son y yo mira no hemos llegado a un acuerdo señora lópez de ocariz no hemos llegado a un acuerdo porque para mí sí que eran diferentes las dos propuestas hay una frase hay quien ha hablado del desembarco de normandia no voy a citar a churchill porque luego

el señor uribe etxebarria pero voy a citar a einstein que decía que la locura es seguir haciendo lo mismo

si no aceptamos que hay un problema y que ese problema que no es el problema de que nos estemos convirtiendo en magaluf que no lo es ni en estepona como decía el señor retortillo en otra comparecencia ni que estemos buscando el turismo de sol y playa ni que vaya a tirar toda la industria y nos vamos a convertir en una economía

pero el problema incipiente e innegable es que algunas externalidades negativas del turismo están perjudicando la calidad de vida de cada vez un mayor número de ciudadanos y ciudadanas de este país

a día de hoy está focalizado pero hay que reconocerlo porque reconocerlo es el primer paso para corregirlo

decir que el turismo es el apocalipsis y que no venga nadie porque el turismo nos gusta a todos y nos gusta hacer turismo enriquece a las personas y las economías y queremos un turismo controlado

pero no acepto ni el catastrofismo ni tampoco el negacionismo de una serie de problemas que exigen además un cambio de rumbo porque mire le voy a dar un dato y le estoy

de los interlocutores en donostia el año pasado creció el número de turistas un diez por ciento anual eso es sostenible

habrá que hacer algo para redireccionar esos flujos habrá que llegar un momento que se diga que hasta aquí hemos llegado en determinados aspectos porque

el problema no es que la real juegue todas las semanas en europa ojalá

el problema es tener a la real sociedad entrenando en el piso de abajo y en el piso de arriba todos los días

ruidos molestias trasiegos aglomeraciones

no vienen franceses a donostia vienen ciudadanos vascos de baiona o qué muchos de ellos hablan francés ya que mencionamos iparralde

ejemplo a título ilustrativo iparralde es un ejemplo de cómo se vende el país y a veces yo creo que hasta se pasan y entrar a una tienda de iparralde tiene un punto kitch pero ahí ves toros ves jamones ves txapelas ves lauburus ves ikurriñas te lo meten por los ojos porque ahí lo que se vende es pays basque

porque saben precisamente que lo que venden es eso y lo que no hay en ningún otro sitio es eso igual que si vas a escocia

aunque haya veinte porque eso es lo que tú ofertas y desde euskal herria

igual no hay que por qué caer en ese tipismo que puede llegar a ser un poco excesivo pero sí tenemos que vender país porque esos seis mil que se han bajado de los cruceros si hacen un diario de su viaje probablemente pongan

he comido tres pinchos he estado en el guggenheim

eso no es turismo de calidad turismo de calidad no es que venga la gente a dejarse pasta puede haber turismo de calidad de gente de pasta

turismo de calidad es el que va demandando algo distinto y el que aprecia eso distinto y que no trata de alterarlo y acomodar el destino a sus necesidades sino que va a conocer y luego habrá sitios donde se hagan

para el ocio y demás pero no es la oferta de nuestro modelo

por eso ni catastrofismo ni negacionismo si no se reconoce al menos implícitamente que hay un problema puntual pero creciente y que eso exige un cambio en las políticas no vamos a llegar a acuerdos si eso se reconoce ya digo no pido autoflagelación autocrítica sino un redundante aunque sea implícito

y se oferta trabajar conjuntamente ahí estaremos porque no nos interesa hacer de esto

para precisamente obtener las ventajas económicas culturales sociales de todo tipo del turismo sin que el turismo

gracias presidenta señor casanova efectivamente

yo no niego que hay que vender país yo no niego que hay que vender euskadi yo no niego

ni lo niego yo ni lo niega el plan estratégico ni lo niega la ley de turismo ni lo niega el plan director de turismo sobre las bases sobre las cuales está trabajando el gobierno vasco por lo tanto como suele decir

garcía porque ella es la que ha traído aquí la iniciativa del año dos mil diecisiete

con un discurso porque nos ha leído toda su moción que la realizó y la efectuó en el año dos mil diecisiete para luego acabar concluyendo después de ese diagnóstico que yo entiendo que era irreal además se lo comentó también como le digo el señor consejero entonces retortillo

todos los males de ese turismo insostenible de una malísima gestión del gobierno vasco dice usted

trabajar en la consecución de los principios emanados de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible de las naciones unidas a la realidad de los agentes turísticos de euskadi

solucionar todos los problemas que usted nos ha venido a contar aquí y yo le digo que frente a esta moción que

en este turismo sostenible por toda la ordenación a través del plan estratégico del plan director y de la ley de turismo yo le vengo a decir que hemos planteado una enmienda transaccional de cinco puntos que recoge la planificación que ustedes muy sutilmente le habían quitado al partido popular

en una de las resoluciones de las juntas generales de gipuzkoa en esa ponencia que hablaba de la planificación

se lo tacho y digo que es que se parece mi enmienda transada con bildu a la que han hecho el partido

señora garcía como un huevo una castaña en nada

en nada excepto el último punto el último punto nada más

cómo puede decir que se parecen en qué si no partimos de un diagnóstico igual

es que es imposible por mucho que queramos llegar a un acuerdo amplio qué más quisiera yo que llegar a un acuerdo unánime con todos los grupos para el tema de cómo avanzar y cómo orientar

como un turismo sostenible qué más quisiera yo por la cuenta que nos trae como partido que sustentamos al gobierno pero es que es imposible están ustedes poniendo trampas continuamente

pues no llegaremos a un acuerdo en esos términos porque usted le vuelvo a repetir hace titulares magníficos vamos a intentar el turismo sostenible y luego

no me responde usted usted ha dicho en su discurso y si no lo podrá leer en unos días ha venido a decir que en la parte vieja de donostia nos habíamos cargado el patrimonio histórico yo le he dicho

que nos ha resultado a los donostiarras así como que mira algo nos hemos cargado y no me he dado cuenta

no acabo de pillarlo así que lo que si le vuelvo a pedir es segundo el tema de los alquileres oiga no se equivoque

hasta cuando había terrorismo y no venían turistas hasta cuando algunos no podíamos ni siquiera pasearnos por la parte vieja porque el terrorismo nos impedía acudir a esa zona y los alquileres ya eran caros

pues hombre gracia poca no ninguna ninguna y entonces los alquileres en la parte vieja señora garcía se lo puedo asegurar eran carísimos la media más alta de españa y le vuelvo a repetir el precio de la vivienda también era caro en el resto de donostia

a alza a barrios como alza comprende usted por eso le decía que no focalicemos tanto en que el turismo es

en la cual todo es terrorífico y además es el mal
en todos isiltasuna garcía anderea isiltasuna mesedez un poco de respeto porque yo he estado calladita y usted no

respéteme un poquito ya sé que no le gusta pero oiga donde la dan las tomas así que yo lo que sí a explicar y exponer es que ojalá nos encontremos en el camino un buen día pero con elkarrekin podemos o con un grupo juntero

que niega las conclusiones generales de una ponencia sobre el turismo como la que hubo en las juntas generales de gipuzkoa sin poner ni siquiera un voto particular

sea otra y seguramente podremos encontrarnos en el camino nada más y gracias eskerrik asko

tiene razón señora garcía los dos textos son muy parecidos

le estoy dando la razón no sé encima ah bueno

pero los discursos que sustentan esos dos textos que son muy parecidos son muy diferentes y desde luego lo que nosotros no aceptamos es criticar al gobierno porque no está haciendo cuando he intentado demostrar en mi primera intervención

y lo está haciendo desde hace tiempo de una manera planificada de una manera estudiada y de una manera reflexionada y no solo eso sino también desde un punto de vista operativo en colaboración con el resto de instituciones y el sector y ustedes eso lo niegan

y bueno yo no sé pero yo le iba a decir en la primera intervención pero no me ha dado tiempo algún día no sé de cara al futuro habrá que

habría que definirlo qué es turismo de calidad es turismo es el que más gasta es por tanto igual elitista

lanzo preguntas no afirmaciones es posible conciliar

unos precios asequibles y luego unos salarios muy buenos al personal que trabaja en el ámbito turístico pregunto a modo de reflexión y luego ya hay

en su propuesta que sí me ha llamado la atención usted lo ha citado y lo ha leído de corrido pero bueno dice hacer un turismo y unos viajes

menos masificados y más sostenibles es hoy por hoy una respuesta posible al problema de la difícil compatibilidad entre el crecimiento cuantitativo

hay que tener en cuenta la demanda y vivimos en sociedades libres y los impactos sociales económicos culturales medioambientales negativos que generan los flujos turísticos vale qué es eso de unos viajes más ralentizados y pausados menos masificados y más es hoy por hoy una respuesta posible hacemos un plan estratégico y ponemos una empresa de este tipo

y no quiero ser demagógico pero es verdad lo que le decía la señora

ustedes en su moción y generalmente sobre este tema hablan de generalidades pero luego medidas concretas que sean realistas que sean realizables pues realmente no las vemos por ningún lado sinceramente no las vemos que tengan

y que respeten también una serie de principios regular los flujos de las personas no sé cómo se hace eso ponemos las fronteras

claro es que a uno le viene a la cabeza ese tipo de preguntas cuando se hacen este tipo de afirmaciones y bueno rápidamente y telegráficamente

la colaboración entre aquitania euskadi y nafarroa está el ámbito turístico la sidrería esa de la que habla usted en bilbao no es tampoco de toda la vida

gaztelugatxe pues sí hay que regular ya hay unos tickets y bueno pues se puede regular el flujo de personas por día etcétera etcétera pero bueno

pero bueno ya le he comentado lo que ocurre también con los museos con los parques con los acuarios todos aquellos lugares que

un cierto atractivo de la parte vieja de donostia pues ya le digo ya se está ocupando

igual quizá habría que prestar cierta atención a algunas fiestas que se celebran o que se organizan en el puerto por ejemplo en algunas fechas esas sí causan suciedad ruido molestias etcétera etcétera

nosotros tampoco negamos en absoluto que haya efectos negativos precisamente yo creo que si se leen los textos del gobierno

en aprovechar el turismo como una fuente de riqueza para crear economía para crear empleo con una serie de valores principios en fin

entonces efectivamente hay que paliar en la medida de lo posible esos efectos negativos y yo creo que en eso estamos

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok egun on también a las personas invitadas que asisten a este debate representantes de asociaciones sobrevivientes

antes de iniciar el debate quiero manifestaros el reconocimiento de todo elkarrekin podemos por vuestra valentía

para acabar con la violencia sexual hacia niños niñas y adolescentes

me saquen una foto a mí os agrademos sinceramente

unas situaciones tan difíciles para vosotros y vosotras para vuestras familias y para la sociedad estamos seguras de que es el camino correcto para sanar heridas

gracias de corazón esta iniciativa y el debate político que hoy

de vuestras reflexiones demandas y propuestas nos sentimos realmente satisfechas con el acuerdo unánime que parece que vamos a firmar en el día de hoy porque hoy en el parlamento vamos a dar un gran salto cualitativo sin precedentes en la forma en el que el abuso sexual infantil

política vasca hoy con esta proposición no de ley completa y muy especialmente con la creación de una ponencia para la prevención la memoria la verdad y la reparación la violencia sexual va a ser tratada verdaderamente como lo que es una vulneración de derechos humanos que debe ocupar un lugar central en la agenda política vasca

políticas e institucionales el camino por avanzar hacia una sociedad más justa más igualitaria por construir y defender una convivencia democrática y una sociedad

es absolutamente imprescindible que afrontemos todas la violencias que son bases ideológicas culturales y simbólicas que se producen en nuestra sociedad contra aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad y el abuso sexual infantil

simbólicos e ideológicos atraviesan a toda la sociedad no se pueden analizar las violencias en la infancia y adolescencia aisladas de las desigualdades presentes en nuestra sociedad vivimos en un modelo social adulto céntrico y patriarcal esto quiere decir que es que en nuestra se pone a las personas adultas en general y a los hombres adultos en particular

y eso hace que estén naturalizados y legitimados algunos comportamientos abusivos hacia quienes se consideran inferiores en este caso hacia la infancia y la adolescencia

una más de las violencias que generan y al mismo tiempo perpetúan las desigualdades por motivos de género y por motivo de generaciones que se entrecruzan y están presentes en absolutamente todos los ámbitos de la sociedad como sociedad tenemos que mirarnos al espejo sin engaños hay que cantarse las verdades pero no para lamentarnos sino para afrontarlas con responsabilidad

de algunas personas enfermas no son episodios aislados esto está más extendido de lo que nos gustaría el abuso sexual infantil forma parte de una violencia estructural y no puede ni debe quedar enterrado en el pasado

y los dolores de hogares y de historias familiares hoy por hoy la ley establece unos plazos que no siempre responden a las posibilidades y los procesos de las personas que han padecido este tipo de violencia sexual

y de la sociedad para escuchar arropar y apoyar a las víctimas para hablar y contar hay que tener confianza de que vas a ser escuchada y abrazada

una frase corta pero firme y contundente yo sí te creo

está repleta de confianza y rompe con siglos de estigma de poner en duda de forma sistemática la palabra de las víctimas

debe retumbar en instituciones y en toda la sociedad debe ser nuestra guía para escuchar a niñas niños y adolescentes y a partir de hoy

a las personas adultas que no pudieron hablar o no se les dio la oportunidad para poder contar para la justicia los posibles delitos han prescrito

que no podrán tener recorrido judicial sin embargo un grupo de vecinos y vecinas de deusto en bilbao hace unos meses en la manifestación que se realizó allí portaban una pancarta en la que se podía leer la verdad no prescribe

de este acuerdo se va a abrir en el parlamento un espacio para la escucha de vulneraciones para que la verdad no prescriba para

vamos a conocer la verdad de quienes fueron niñas y niños y hoy son personas adultas sobrevivientes vamos a hacer un esfuerzo para construir memoria colectiva

y de alguna manera vamos a reparar el daño de la violencia y también del daño que produce

bien por omisión de forma activa o pasiva que ejercieron las instituciones y el mundo adulto que no supieron escuchar y proteger y bien porque no tenemos las estructuras suficientes para que los niños y niñas que fueron

sobre abusos sexuales a la infancia en este pleno nosotras hemos traído desde elkarrekin podemos varias iniciativas y se han logrado algunos acuerdos unánimes

nosotras presentamos una iniciativa para crear una ponencia sobre las políticas contra la violencia hacia niñas niños y adolescentes lamentablemente hubo partidos

ese cinco de junio de dos mil diecisiete hace dos años en la comisión

yo decía vamos a seguir impulsando las veces que haga falta iniciativas para que las políticas de euskadi en esta materia estén a la altura de la gravedad del problema

pero quiero poner en valor el acuerdo que finalmente se acordó en aquel momento porque nosotras pensábamos que era mejor que nada llegar a algún acuerdo aunque fuera pequeño así que fuimos

al gobierno a que en la mayor brevedad posible

sobre los casos de abusos sexual y tal y como dije aquel día y seguimos trabajando hoy volvemos a reclamar al gobierno que se cumplan aquellas iniciativas que aquí se aprobaron y que todavía

no se han puesto en marcha han pasado dos años y seguimos sin que lo tengan a bien así que instamos en esta iniciativa también al gobierno vasco en que

en su momento en esta ponencia vamos a trabajar la memoria la verdad

y además ahora no tienen posibilidades de un procedimiento judicial y eso es una

al futuro y será un elemento a tener en cuenta de ahora en adelante pero ojo la creación de esta ponencia no exime de ninguna responsabilidad al gobierno vasco

ni tampoco con sus actuaciones actuales es por ello que nosotras desde elkarrekin podemos vamos a seguir haciendo seguimiento a las actuaciones del gobierno vasco y presentando iniciativas porque queremos que se afronte el pasado que por eso hacemos la ponencia

reales para las niñas y niños del presente y del futuro termino y quiero cerrar este punto con la palabra como he comenzado

que ha sido capaz de acompañarles y arroparles y también celebrando este acuerdo que no es nuestro acuerdo sino que es el vuestro el pleno del parlamento hoy

que se constituirá en el seno de la comisión de derechos humanos e igualdad para que a través de los relatos y la verdad de las víctimas de abusos sexuales prescritos en el ámbito judicial

actores involucrados se elabore un estudio en el plazo de seis meses

intensamente la ponencia para que tenga los mejores resultados posibles y vamos a seguir trabajando en todos los ámbitos e instituciones para que la prevención y erradicación de las violencias

sea una cuestión prioritaria en la agenda política vasca eskerrik asko y esto es para vosotras

que tengo que deciros que bajo muy nerviosa

por la importancia que tiene el debate que estamos teniendo hoy por la importancia del acuerdo al que hemos llegado y me siento la verdad que muy afortunada de poder ser la representante de eh bildu a la hora de daros las gracias por el trabajo que

hasta aquí que nos ha traído a este consenso y que nos va a llevar a un trabajo muy duro muy arduo pero

nos comentaba en el grupo que la periodista mirentxu purroy ya hace unos años en un reportaje que hizo en la tele sobre la ablación ella pidió encarecidamente cuando estaba presentando ese documental

que iba a ser una imagen extremadamente dura pero que por favor no se mirase al otro lado para que fuéramos conscientes de lo que estaba ocurriendo y le decía ahora a madalen que quería utilizar esa idea que nos comentó y me decía

que ella se obligó a mirar en ese momento cuando mirentxu hizo esa petición y que se le quedaron clavadas esas imágenes yo creo que hoy

lo que nosotras estamos poniendo encima de la mesa es esa petición que mantengamos los ojos abiertos y que no miremos a otro lado sobre esta realidad que yo creo

por lo doloroso por lo violento que ha sido y es hemos decidido mirar a otro lugar por intentar cuidarnos

víctimas por intentar pasar adelante con lo que estaba ocurriendo en esta sociedad y aquí estamos

y hoy lo que hacemos es esa petición nos pedimos a todas lo mismo

hoy no es día de echarnos flores ni de celebrar el acuerdo sino que es un deber que teníamos

pero aquí estamos aquí estamos a vuestro lado

no vamos a volver a mirar a otro lado porque es una situación que existe en la escuela

en casa y tenemos el deber de ver de analizar y de reformular qué es lo que hemos estado haciendo hasta ahora qué es lo que hemos estado haciendo bien pero sobre todo

y sois vosotras las asociaciones las personas que fuisteis víctimas y que estáis trabajando todavía hoy para interpelarnos

es por vosotras y vosotros que agarramos este reto porque me parece que es un reto enorme el que nos queda ahora entre manos aquí en el parlamento a las personas que llevaremos a cabo este trabajo

todo por construir verdad justicia reparación y garantías de no repetición son palabras que nos hemos aprendido de memoria pero que

mucho de lo que todavía tenemos que hacer con vosotras y con vosotros hori izango da lan hau norabidetuko duen ardatza egia

la verdad no prescribe nosotras y nosotros os creemos y con esa idea es con la que iremos

a escuchar a proponer y a cambiarlo todo eskerrik asko bihotzez eskerrik asko etxebarrieta

gracias presidenta y buenas tardes en primer lugar agradecer a quienes hoy desde la generosidad han decidido

y sobre todo emplazarnos a los que estamos aquí y a quienes formaremos parte de esa ponencia a trabajar una vez más la sociedad ha ido por delante de la política y hoy nos encontramos en este pleno

puesto deberes el grupo socialista entiende que este no es un debate de siglas no es un debate de partidos políticos aunque es verdad y debemos reconocer que es para esto

estamos ante un debate en el que después de haber escuchado a la señora etxebarrieta poco tendría que añadir porque comparto el cien por ciento de lo que ha dicho en el tono y en las formas

como decía estamos ante un debate que ha sido invisible durante demasiado tiempo

a niños y niñas desde luego es hablar de culpables culpables que estaban y están en casa en la escuela en la iglesia esa de la que costaba mucho hablar

todos aquellos que debían y debíamos proteger sin embargo a veces causaban y causan la mayor de las violencias el silencio y la invisibilidad

aunque los adultos a veces lo intuimos aunque a veces vemos sufrir durante mucho tiempo el silencio durante demasiado tiempo ha sido el protagonista

y terminar sin querer protegiendo a sus abusadores desde hace un tiempo las víctimas se atreven a dar voz lo mismo ocurrió con la violencia hacia las mujeres hasta que no llegó la visibilidad no llegó la verdadera conciencia ciudadana y política porque hoy existe pero llevaba existiendo mucho tiempo

pero supeditada a la protección y tutela de otras personas la infancia es un bien valioso para la sociedad pero a la vez y se mantienen al arbitrio de los mayores que como ya hemos dicho no siempre son garantías de amparo tal y como planteaban los grupos proponentes en su iniciativa original

se reconoce lo vivido se condena lo sucedido y desde luego hoy nos comprometemos a trabajar para que las víctimas logren la verdad justicia y reparación que merecen

de lo que pasaba solo el quince por ciento de los casos se denuncia a la policía de ese quince

el proceso judicial dura como promedio tres años en algunos casos se llega a los cinco el abuso sexual dura como promedio cuatro años te atormenta te tortura durante toda la vida si no se trata

el ochenta y seis por ciento de los casos el menor tiene que declarar en sesiones plenarias en juicios a puerta abierta delante de tres jueces y también del presunto autor de los hechos en la política y en la ley las cosas van demasiado despacio otras imperdonablemente despacio la lucha por dar a las víctimas infantiles de abusos sexuales es una cuestión de la política y es más que eso porque tiene que ver con la humanidad el sistema creado específicamente para proteger a los más vulnerables hace muchísimo tiempo que permanece roto y ya no sirve queremos crear espacios seguros estén donde estén libres de abusos para nuestros niños y niñas que euskadi sea un lugar

sabemos lo que hace falta pero sobre todo pueden ayudarnos las víctimas a acertar con la implantación de esas medidas que todos reconocemos que debemos poner en marcha y para eso es para lo que debe servir esa ponencia y también las organizaciones y asociaciones que han trabajado en la lucha contra la violencia sexual contra los menores

serán posibles desde nuestro nivel competencial y eso haremos y para otras tendremos que presionar a las instituciones para conseguirlo tiene que ser un objetivo prioritario es fundamental una formación obligatoria unos protocolos y una reforma profunda del proceso judicial para que en los casos de abuso sexual infantil se respete de verdad los derechos del niño y también sus necesidades particulares que haya juzgados específicos con jueces preparados

en privado con la presunción de que se está diciendo la verdad cuando se trate de los niños hay que dejar de distinguir

todos sabemos lo que es los socialistas nos comprometemos parece que las urnas dieron al partido socialista obrero español el gobierno de españa

como prioridad la aprobación de una ley que erradique la violencia contra los menores y adolescentes

tal y como ha sugerido en dos ocasiones el comité de los derechos del niño

que comparecerán en esa ponencia serán los mejores recursos en la tarea de cambiar las cosas a mejor de forma permanente para los niños y niñas de nuestro país la posición no solo de la política sino de la sociedad no puede ser nunca más el no hablar el no ver el no oír el hacer como que no vemos lo que de verdad todos sabemos que existe

porque hay muchos adultos interesados en que esto se mantenga porque se ha transmitido de generación en generación porque es un tabú porque forma parte de una cultura hipócrita y el reconocimiento no provoca culpa y vergüenza no se habla del tema vamos a romper la conspiración del silencio creada

como ocurría en la iglesia porque son comunes allá donde hay una jerarquía de poder donde se puede abusar con sensación de impunidad ahora están de actualidad

pero hay abusos en la familia en las escuelas en el ámbito del deporte como en cualquier lugar donde hay una jerarquía de poder el problema

en realidad no hay registros fiables pero no se trata de casos aislados sino que es una realidad infinitamente grave y real

cuesta mucho que el menor de edad se atreva a denunciar su situación incluso en casos donde

con la explotación sexual de los mismos eso está cambiando es verdad con las redes sociales pues antes solo se tenía acceso a los menores

pero hoy hay un peligro al otro lado de la pantalla y es verdad que debemos ponernos todos a trabajar en poner medidas que esto solucione miedo vergüenza o culpabilidad paralizan a los menores que sufren abusos que se ven atrapados entre la presión de los compañeros los tabús sobre la sexualidad hacia el superior el entrenador o la pasión por el deporte que practican por eso nuestra demanda principal es poder conocer en mayor profundidad el alcance de la situación sabemos que estamos ante la punta de un iceberg que desconocemos

y con tanto daño contra nuestros niños y niñas y hay que empezar a hablar para animar a los menores a denunciar situaciones

nos falta preocupación nos falta compromiso falta formación sobre este fenómeno porque para empezar siempre se ha dado un enfoque de que se trata de un delito que lo es pero se ha entendido que también es una grave violación de los derechos humanos y por lo tanto los estados y los gobiernos debieran poner los medios adecuados para su prevención nos toca hacer frente a una responsabilidad infinita histórica y silenciada la de los abusos sexuales a la infancia dar voz visibilidad verdad justicia y memoria a sus historias de daño y de violencia

aprender con las organizaciones que les han tratado y acompañado y tomar medidas políticas

la pasada la presente y la futura nadie puede seguir mirando para otro lado como con tantas otras cosas mirar para otro lado siempre tiene una factura enorme a pagar y es en este caso

es un orgullo poder formar parte de una ponencia como la que hoy se va a apoyar y espero que entre todos lejos de las siglas de los intereses partidistas seamos capaces de formar parte de la solución

relativa a las violencias sexuales contra la infancia y la adolescencia y tener en cuenta también la proposición no de ley aprobada en la comisión de derechos humanos e igualdad el cinco de junio de dos mil diecisiete relativa

de una ponencia con el encargo de realizar un informe de evaluación con recomendaciones sobre las políticas contra la violencia hacia niñas niños y adolescentes además tener en cuenta el trabajo y los datos obtenidos por el servicio

y solicitar a los medios de comunicación que cuando informen sobre quebrantamientos de los derechos de menores mencionen dicho servicio

lehendakari consejeras señorías bueno ya se han dado muchos argumentos voy a ser breve nunca más o basta ya hemos empleado esas expresiones definitivas en relación con lo que hemos sufrido con la violencia que este país otras expresiones de violencia hemos sufrido y han sido

gráficas expresiones contundentes expresiones importantes igual de contundentes tenemos que ser también con la violencia sexual en este caso

mi grupo votará lógicamente a favor de la iniciativa planteada que se refiere a abordar en el seno de la comisión de derechos humanos un trabajo

y sobre todo de sus terribles consecuencias y abordar ese tema para que eso no se vuelva nunca más a producir

aprobación de las proposiciones no de ley de dos mil diecisiete y dos mil dieciocho ya ponía un camino de respuesta y actuación institucional y que desde este parlamento bien podíamos seguir y contemplar y analizar los frutos

que también existían grupos de trabajo e iniciativas en marcha efectivamente la propia

poner en valor en primer lugar a las organizaciones entidades las personas que están trabajando en relación con estas cuestiones con los abusos sexuales a menores

y dar poner deberes y poner trabajo a los poderes públicos cada uno en su ámbito de actuación y de su competencia pues para establecer

detectar proteger a los menores hablar de resarcir incluso reforzar protocolos de inspección hablábamos de la educación es decir

de ninguna manera nos vamos a negar a seguir conformando aquí ahora en el parlamento y en la comisión de derechos humanos ámbitos de análisis que rechacen

situaciones esos abiertos comportamientos y construyan

más desde un parlamento modelos y hábitos sociales hábitos jurídicos hábitos culturales educativos que preserven a los jóvenes que preserven a los niños y a las niñas de los peligros del abuso de los peligros del miedo

crueldad bien yo creo que la ponencia podemos correr el riesgo de repetir análisis que ya se están haciendo

de nuestro plan de trabajo del plan de trabajo de los objetivos efectivamente de la metodología de la seriedad y del rigor con que abordemos

completará también actuaciones y trabajos que ya llevan haciendo muchas instituciones muchos grupos de trabajo muchas asociaciones y que en ese sentido

no repetirnos sino complementar o abrir

bien todos queremos que esas actitudes nunca más se repitan ya que avergüenzan a cualquier sociedad por ello trabajaremos

última reflexión qué fácil y emocionante es para algunos hablar de deslegitimar cualquier tipo de violencia sexual

y la adolescencia qué fácil pero qué difícil les resulta deslegitimar esa violencia terrorista que acabó con la vida

la vida de muchos niños y adolescentes me gustaría que esta reflexión sirviera efectivamente hablamos de infancia y adolescencia
hablamos de vidas arruinadas y hablamos de asignaturas pendientes muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

compañeros de otros grupos hemos presentado una proposición no de ley

de obstrucción a la labor del gobierno vasco por los grupos de la oposición y nosotros lo que le estamos pidiendo al gobierno vasco es que cumpla sus propias leyes las que ellos aprueban incluso las que se aprueban sin negociar ni una coma con nadie

porque esa es la labor del gobierno el labor del gobierno es

incluidas las que aprueba el gobierno vasco y en este caso nos estamos refiriendo a la ley de prórroga presupuestaria nos estamos refiriendo a las partidas nominales

y nos estamos refiriendo a todas ellas a todas las que venían

inicialmente de los grupos que apoyan al gobierno vasco y las que mediante enmiendas se aprobaron en ese proyecto de presupuestos en la ley de presupuestos

de todas ellas y claro cuando alguien se queja de obstrucción y lo que hace es incumplir sus propias leyes

o a lo mejor es que asistimos a un gobierno tan prepotente tan prepotente que como nos dijo la señora consejera

nos dice el diez de enero de dos mil diecinueve es decir cuando estábamos en prorroga de presupuestos

su propuesta estaba establecida en el presupuesto que no se aprobó oiga ya estaba vigente la prórroga presupuestaria señora consejera

desde el día uno de enero no porque el gobierno lo hubiera decidido no sé si querido

qué dicen las partidas que tiene usted en su departamento en este caso concreto en respuesta suya por escrito

el veintitrés de abril dice que son ciento noventa y siete mil euros

es lo que tiene usted que cumplir no me diga que era extraordinario cómo que es extraordinario oiga no ninguna partida es extraordinaria

de ningún tipo o que recibamos respecto a otro departamento

que nos han sacado de la lista y han dado a otras asociaciones que no estaban en la lista pero qué clase de gobierno vasco tenemos

porque además hace falta tener valor no hacía falta que en las leyes de prórroga de presupuestos ustedes nos dijeron

como nos dijeron en la ley dos barra dos mil diecinueve

disposición adicional segunda en particular se entenderán prorrogadas las autorizaciones de gasto destinadas a subvenciones que figuren nominativamente asignadas en los presupuestos generales de la comunidad de euskadi

dieciocho siempre y cuando no financien programas y actuaciones que por su naturaleza debieron finalizar en dicho ejercicio

este artículo era innecesario

los letrados del gobierno vasco cuando ustedes lo trajeron en el decreto legislativo uno barra dos mil once de régimen presupuestario de euskadi

ya estaba no hacía falta pero lo pusieron expresamente

y lo están incumpliendo y qué hacen los grupos que apoyan al gobierno porque nosotros lo que le estamos pidiendo al gobierno es que cumpla su ley de prórroga presupuestaria los grupos que apoyan al gobierno enmiendan

de prórroga presupuestaria y qué nos dicen

les han hecho firmar a los parlamentarios del partido socialista y del partido nacionalista vasco en fin de esto algo saben

el parlamento vasco insta al gobierno vasco a prorrogar las autorizaciones

esto es ilegal el gobierno vasco no prorroga nada

cuando hay prórroga presupuestaria cómo que el parlamento vasco le insta al gobierno a prorrogar no sé qué partidas de gasto

una cámara legislativa se hacen leyes para que el gobierno las cumpla hombre y cuando además esas leyes responden

no solo se está incumpliendo la ley se está incumpliendo el acuerdo y quiero recordarles a los señores del partido nacionalista vasco que hace ya cinco meses les dijimos que para pactar y llegar a acuerdos

hay que hacerlo que gente que cumple los acuerdos que firma

pretender que los demás sigan pactando o acordando nosotros

al gobierno vasco a que gobierne con la ley en la mano con la que ustedes aprobaron eskerrik asko damborenea jauna

pastor jauna

gracias presidente seré breve porque

que no ha hablado mucho de educación yo me voy a centrar más en ese tema

económico para nosotros la educación que es también de lo que estamos hablando

y esencial para el progreso de la sociedad porque define la sociedad a la que pertenecemos además de constituir un impulso en el crecimiento y en el avance del país y por ello

la universidad a distancia de álava debiera de ser una prioridad para todos desde luego para nosotros lo es es un método de enseñanza que facilita el estudio

y compatibilizar su vida laboral con sus estudios

grados que se imparten y además es intergeneracional no estamos hablando de un colectivo específico de ciudadanos en edad escolar hay mucha gente de edad avanzada incluso que se matricula en la

y es cierto que ha habido una prórroga presupuestaria pero tal y como se refiere a la proposición no de ley de la disposición segunda de la ley dos barra diecinueve

destinadas a subvenciones que figuren nominativamente asignadas en los presupuestos generales de la comunidad autónoma de euskadi

siempre y cuando no financien programas o actuaciones que por su naturaleza debieron finalizar en dicho

bien eso es lo que dice y eso es lo que viene a decir también la enmienda que hemos presentado con el grupo nacionalista pero me gustaría recordarle al señor damborenea que es precisamente en el gobierno de javier de andrés en la diputación foral de álava un gobierno del partido popular cuando se recorta el presupuesto dejando un déficit de cien mil euros que es el sigue manteniéndose hasta la fecha

además he de recordar que siendo isabel celaá consejera de educación del gobierno vasco

porque estábamos fuera en el gobierno anterior en este caso el gobierno vasco es miembro del patronato y deberá decidir qué es

si bajar y reducir los servicios que la universidad de distancia de álava oferta y ofrece como reducir horarios clases tutorías

a esta situación desde luego no solo es el gobierno vasco el que ha de ser partícipe de esta situación y ser el responsable de dar una solución a este problema

en el patronato y por tanto en la solución de este conflicto todas las instituciones alavesas junto con el gobierno vasco deberán dar una solución y subvencionar la uned de la forma más adecuada y sostenible posible

los socialistas no queremos reducir ni disminuir los servicios que la universidad de distancia de álava ofrece y oferta sino que además aportamos para que esos servicios mejoren todos los estudiantes tienen que tener garantizados una educación de calidad y es nuestra obligación ofertarla

una educación universal de calidad en todo lugar y bajo cualquier circunstancia y debemos tener como objeto la atención preferente en la distribución de los recursos destinados

y quería aprovechar esta oportunidad para hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas y a todas las instituciones porque me da la impresión que en algunos partidos y en algunas instituciones se percibe a la unidad a la universidad de educación a distancia como una especie de elemento al país y por lo tanto se le da una consideración que creo que debiera de ser mucho más afectuosa y más cercana y en esa universidad quiero recordar

como en álava como en gipuzkoa en sus diferentes centros se matriculan miles y miles de ciudadanos vascos de todas las edades

porque de otra forma ni podrían obtener el título o bien por la edad o bien por el trabajo y por lo tanto quiero decir que independientemente de la titularidad si es una universidad

o no lo es cumple un servicio también para la comunidad autónoma de euskadi y quiero que este llamamiento sirva para todos los que estamos en esta cámara no lo consideremos un ente ajeno al país porque no lo es

que financia desde los servicios centrales y tiene otros complementarios

están los ayuntamientos no quisiera que pasase como durante muchos años pasó con la universidad a distancia

yo me pasé dieciséis años de alcalde peleando con ayuntamientos

para convencerles de que era importante necesario y conveniente aportar fondos a aquella institución

que la institución de la universidad de educación a distancia no se merece que nos tengamos que ver cada poco tiempo en discusiones presupuestarias para garantizar
la vida académica de esta institución eskerrik asko pastor jauna eusko abertzaleak

sendotzeko ere relaciones entre universidad y empresa internacionalización relaciones con la sociedad impulso a los estudios en euskera son solo algunos de los puntos en los que profundiza este plan cuyo centro cuya mirada está puesta principalmente en euskadi universidad del país vasco

universidad de deusto son nuestras universidades las que componen nuestro sistema de universidades vasco

las universidades por tanto de los vascos y de las vascas ahora bien pasando al segundo de los puntos que comentaba al inicio de mi intervención está el relativo a la situación

y después cuenta con una amplia red de centros asociados a lo largo del estado y también fuera de este en concreto en euskadi se compone de tres en portugalete en bergara y también

el objetivo de esto centros asociados no es otro que el de apoyar la enseñanzas que imparte la uned y también dar apoyo a estudiantes de forma presencial ya que

ofrecer estudios universitarios a distancia también cuenta con estos centros para poderlo hacer

estos organismos son autónomos dependen de su sede central en madrid si bien hay que decir que para temas académicos lo hacen al completo de madrid y por supuesto también están patrocinados por corporaciones y entidades públicas y privadas que apoyan económicamente

y que pese a no ser una financiación directa porque esta le compete insisto al ministerio

el gobierno vasco apoya de esta forma y no es otra que la del convenio de colaboración que así está plasmado en los presupuestos de la comunidad autónoma del país vasco

no está regido por criterios académicos de nuestro sistema criterios académicos que se especifican de forma más profunda

del sistema universitario vasco ni tampoco

de euskadi ni mucho menos cuando hablamos de estudios o al impulso de estudios en euskera por lo tanto y podemos decir

no tiene ni coordinación ni dependencia orgánica del gobierno vasco ni en términos legales ni tampoco en términos académicos

que permiten articular y vertebrar también enseñanzas universitarias presenciales como son títulos reglados formación continua y extensión universitaria en cuanto a la financiación propia de la uned creo que es importante destacar cómo se financian estos centros asociados porque la partida destinada por parte del gobierno vasco y el departamento de educación en los presupuestos

si bien cuenta con tres centros asociados y que como sabrán si han acudido al convenio firmado por ambas partes se divide en dos formas una aportación basal que consta del treinta por ciento

y una segunda parte que es el setenta por ciento restante que se divide en función de la matriculación existente en cada uno de los centros en estudios oficiales y creo que esto es importante y que pos eso existen diferencias dentro de euskadi entre centros asociados como puede ser portugalete bergara o vitoria gasteiz criterios por cierto

que son susceptibles de ser modificados a posteriori siempre y cuando garanticen que la igualdad de trato entre todos los alumnos de uned euskadi en euskadi

nahiko genuke recordarán que a principios de año el gobierno vasco comunicó a uned euskadi en concreto a uned vitoria gasteiz cual era la partida destinada en los presupuestos que era de cuatrocientos mil euros y aquí creo que es importante y se ha comentado ya y por eso

lo que se dice en la disposición adicional segunda de la ley dos barra dos mil diecinueve

y nosotros ya que en ella ya lo han leído ustedes pero bueno en este caso yo también la coletilla final dice que siempre y cuando no financien programas o actuaciones que se

para ampliarla supone una ampliación puntual contextualizada en el año dos mil dieciocho por lo tanto

por tanto nosotros nos agarraremos a eso en cualquiera de los casos señor damborenea permítame decirle que ustedes podrían haber hecho como hicieron en dos mil dieciocho podrían haber propuesto modificar el presupuesto dos mil diecinueve y no lo hicieron tendrán sus razones usted

en cualquiera de los casos nosotros mantendremos la enmienda expuesta y nada más besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

prórroga presupuestaria y de la ley bi barra bi mila hemeretzi gero zioan arabako

betetzea ekartze da creo que es un debate mezclado de dos cosas muy diferentes y creo que además visto el perfil de los y las portavoces que vamos a salir aquí

presentado la iniciativa y creo que hacemos un flaco favor a debatir una parte presupuestaria concreta de una pelea que tienen ustedes con lo que se aprobó entre el partido nacionalista vasco y el partido popular en dos mil dieciocho y la ley que se aprobó aquí creo que mezclar ambas cosas utilizar un tema que puede generar consensos aunque vista la intervención del señor álvarez tengo mis dudas que es la

creo que no hacemos un favor al debate lehenik eta behin uned elkarrekin podemosetik beti agertu gara

y rotunda de una universidad pública que también es nuestra que también es vasca que es una universidad de calidad y a distancia y que consigue a unos precios de tasas no muy elevados

y quien quiera también por supuesto estudiando a lo largo de

que tienen un control relativo por parte de lo público y unos precios realmente estratosféricos y creo que más allá de las enmiendas de los grupos en los presupuestos y de este debate que creo mezclado que tenemos hoy en este parlamento

la primera institución que lo debería de hacer porque cumple una función educativa una función social

españolas y también para las vascas que más allá de que además sea una inversión es un coste más que asumible sobre todo para la rentabilidad social que tiene

como se ha explicado ayuntamientos y diputaciones a parte del gobierno vasco también hacen contribuciones a los centros asociados uste dut aitortza publikoa handiagoa behar duela

y aquí sí que me tengo que referir un poco a la intervención del señor álvarez que me ha dejado un poco sorprendido

y en este parlamento tenemos muchos debates muchas veces en abstracto sobre lo que es el autogobierno el autogobierno precisamente es poner el dinero la financiación que tienen los ayuntamientos que tiene la diputación foral de bizkaia la de álava y la de gipuzkoa y la del gobierno vasco al servicio de las necesidades de la gente

universidad que está aquí que cumple una función muy concreta y muy valiosa además de calidad y a unos precios como decía muchísimo más accesibles para la ciudadanía que las universidades privadas que están saliendo como champiñones

trayectoria histórica yo creo que el autogobierno también tiene que servir para eso para mejorar eso

evidentemente pero que el autogobierno tenemos que poner al servicio

también porque si no lo que pasa es que las competencias que tenemos por ejemplo en bilbao las utilizamos para hacer una macroisla de las universidades privadas y tenemos por ejemplo

me dirá quién puede financiar matriculas de seis mil euros el curso y este es un ejemplo

servir junto a otros barrios en bilbao para acoger las distintas facultades de la universidad del país vasco que necesitan expandirse y hacer una ciudad universitaria

están haciendo un mercadeo de universidades privadas de gruesa calidad a precios estratosféricos

y por cierto decía que no estaba la uned en este plan universitario es cierto no está pero tampoco ninguna de estas

alfombra roja todas las facilidades urbanísticas y fiscales del mundo para que vengan a

bizkaia mientras estamos dejando de lado cuántos años hemos tardado en tener la facultad de medicina bueno que todavía no está en marcha las obras cuánto tiempo se ha tardado

tenemos la parte educativa de la justificación de la propuesta del partido popular con la que estamos de acuerdo

absoluto y también al incremento de la financiación así lo hicimos en la comisión de hacienda en el año dos mil dieciocho y en el año dos mil diecinueve a través de enmiendas nuestras a los presupuestos y también

y sobre el tema del presupuesto pues poco que añadir a lo que el señor lo que el compañero julen bollain haya podido

estábamos dispuestos a llegar a acuerdos como seguimos estando siempre que sean acuerdos que beneficien a la mayoría social vasca y no sea un drágala a los postulados de los partidos del gobierno nos abstuvimos también en la ley de acompañamiento dos barra dos mil diecinueve porque a conciencia incluía también además de la subida salarial dos punto veinticinco de funcionarios también

la subida salarial a los altos cargos con la que no estábamos de acuerdo

por lo tanto esta propuesta concreta del pp también nos abstendremos y lo que sí que es verdad y ahí podemos coincidir con el señor damborenea es que el gobierno

pues vamos a ver cómo los partidos que sustentan al gobierno votan en contra de cumplir la ley eso vamos a ver dentro de un ratito

sí y no no solo de la de madrid sino de todas las instituciones vascas

mi grupo ha presentado una proposición no de ley que tiene por título

y pedimos eso todo el presupuesto no solo

todo el presupuesto me hace gracia que usted me diga que el problema de la uned es que

redujo la subvención oiga y nosotros que la hemos subido con ustedes y con estos señores hace dos años

que hoy figura en el presupuesto prorrogado

usted me dice que le preocupa mucho la uned que ha trabajado mucho por la uned oiga señor pastor su gobierno va a pagar

las partidas consignadas hoy en el presupuesto sí o no esto es muy fácil van a cumplir su ley sí o no y señor álvarez hombre hacía tiempo que yo al partido nacionalista vasco no le veía sacar la patita aquí en la tribuna con este sectarismo

y a la upv la universidad de deusto

o qué pasa que la uned no tiene centros en el país vasco pero usted de que planeta está aterrizando oiga que su partido hace tiempo ya que decía que en fin que esto del racismo que nos vuelve aquí a vascos de primera vascos de segunda unas universidades privadas

sin límite y otras públicas como no nos gusta y somos sectarios pues no le damos el dinero que está en los presupuestos consignado

universitario vasco ni cómo se financia todo él ni nada parecido oiga que nuestra proposición

la que aprobaron ustedes la que no nos dejaron negociar ni una coma en la prórroga presupuestaria ustedes la trajeron tal cual

y se la aprobamos eso es lo que estamos planteando aquí lo que se está viendo

pero nos ha quedado muy claro que es que es española es española sabe usted entonces como es española

porque es que claro la financiación del año pasado se agotó en sí misma

se agotó en sí misma el año pasado se agotó en sí misma la de la sabino arana o esa sí

pues a esa y a todas las de la ley eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak pastor jauna ez du hitzik hartu behar

uned vive una situación desde luego de desamparo absoluto y yo creo que es todo lo contrario

lo que desde diputaciones forales también se hace incluso desde ayuntamientos sin ir más lejos del que yo formo parte anualmente dedicamos una partida

o intentan hacer ver desde luego yo no la veo tanto sin olvidar la partida que destina el gobierno vasco anualmente cuatrocientos mil euros y que en ocasiones ha sido ampliada a través de enmiendas y señor damborenea

a mi sí que me preocupa el sistema universitario vasco yo no sé sí a ustedes desde luego escuchándole no lo parece demasiado

muchos aspectos se habla sobre la financiación del sistema universitario

con sede central en madrid y con centros adscritos en euskadi por lo tanto esa es la principal diferencia hablaba usted de que la universidad del país vasco también es española

cuántas sedes o cuantos centros puede tener fuera de nuestro territorio

en cualquiera de los casos me gustaría verle señor damborenea pelear a usted con el mismo ahínco por la financiación de la

de araba porque también revirtiera todo lo que pagan en matrículas al cien por ciento en euskadi ya que a día de hoy solo el cuarenta por ciento de lo mismo se queda en nuestra comunidad y en cualquiera de los casos usted lo que propone y que es únicamente y se lo ha dicho la señora ubera beneficiar al centro adscrito vitoria gasteiz eso provoca automáticamente una discriminación

guipuzcoanos y vizcaínos automáticamente y lo peor es que ustedes vuelven a insistir este año en todo caso

para llevar a cabo esto que no se atrevieron a hacer en el trámite presupuestario allá por noviembre

es que no y es clara en cualquiera de los casos su tren hace algo más de medio año pasó

por noviembre será el tren de los presupuestos de dos mil veinte veremos entonces

veremos entonces qué criterio utilizan para montarse en un vagón u otro

grupo popular de montarse en el vagón y en el tren que mira hacia la euskadi que avanza y no hacia la que hace que retroceda y por último hablaba de que

no no se equivoque lo que vamos a hacer es votar por el cumplimiento de la ley con todos sus preceptos por eso y de ahí nace nuestra enmienda léase la disposición adicional segunda y lo que dice

hablando de sorpresas señor álvarez no ha hablado nada de lo que le he interpelado sobre

la isla de las universidades privadas de bilbao creo que igual yo hablaré

no le importa volviendo

de lo que se destina a la universidad de deusto destina el gobierno vasco

no estamos pidiendo treinta y dos millónes de euros en este caso en las enmiendas del partido popular o las que hicimos nosotros en la comisión de hacienda

en los presupuestos del dos mil diecinueve hay diferencia entre una universidad que tiene si no recuerdo mal lo tengo ahí en el escaño unos

cuántos tiene la uned a cuánto sale el alumno al gobierno vasco

hay que hacer esas cuentas insisto y creo que todo el mundo está de acuerdo que el ministerio

pero vuelvo a insistir cuando volvamos a hablar de autogobierno para qué queremos el autogobierno precisamente entre otras cosas para que por ejemplo la uned esa universidad usted ha dicho tiene tres sedes aquí donde además como bien se lo ha recordado

vascas tenga los mejores recursos las mejores instalaciones la mejor

de aquí y mire el esfuerzo que se le está pidiendo al gobierno

nos preocupa especialmente en el día de hoy porque la justificación de esa iniciativa iba y así lo hemos enfocado a través de la financiación

fíjese el esfuerzo económico en tiempos de bonanza que

en un año de éxito recaudativo de las haciendas forales

ese es el esfuerzo que se está pidiendo que se cumpla yo creo que

el tema de las prioridades eskerrik asko eskerrik asko